autonomoei finantzaziorako sarbidea ahalbidetzea en el mismo sentido el programa

el objetivo de reforzar los instrumentos financieros a favor de la economía productiva

con el fin de intensificar la capacidad financiera de las empresas vascas mediante líneas de crédito avales públicos y apoyo a proyectos

oinarri duen eguna mañana es el día internacional por la justicia social

de la pobreza el pleno empleo y el trabajo digno la igualdad de género y el acceso al bienestar social para todos y todas

eta tamalez bi mila hamaseiko aurreikuspenak ere kolokan daude decimos que las previsiones de recaudación para el dos mil dieciséis también están en entredicho porque se hicieron en octubre basándose en los mismos datos que se utilizaron para la revisión del cierre del dos mil quince

zuhurrak direla de verdad con la actual política fiscal y la situación económica que vivimos considera

el incremento de la recaudación del ejercicio dos mil quince aumentar la recaudación en más de ochocientos ochenta millónes de euros cuando en el dos mil quince no ha llegado ni a trescientos millónes

señor gatzaga este modelo tributario hace aguas por todos los lados aquí hoy nos ha vuelto a repetir las mismas razones que esgrimió el diputado general de bizkaia para explicar el famélico

en la recaudación de su territorio por qué si según ustedes la economía mejora tanto y está todo también

volvemos a constatar que esta no es la prioridad de este gobierno porque una vez más opta por el papel pasivo como si esto no fuera con él una vez más deja claro que su único compromiso

y su compromiso de postal es con el bienestar de la ciudadanía avancen asuman el reto déjense de excusas y miren algo más que afuera porque dentro tenemos herramientas

señorías egun on guztioi así describen la situación los padres y madres de la escuela pública de álava refiriéndose particularmente a vitoria gasteiz se está produciendo un profundo desequilibrio entre las redes pública y concertada de vitoria gasteiz

y particularmente a la población de origen extranjero la red concertada se está convirtiendo

de clase media y media alta de manera que existen centros que están dando la espalda a la compleja realidad social de vitoria gasteiz

como tampoco nunca antes habíamos tenido una constatación publicada al menos de respuestas que obtiene

militante en busca de matrícula para su hijo musulmán y fue a cinco centros educativos concertados y cinco centros le respondieron así en el primero no

en el segundo la religión suya es musulmana ya tiene colegios públicos vaya llévatelo a un centro público en el tercero solo había al principio una plaza de modelo quinientos debería por lo menos haber siete pero

en el cuarto cien por ciento cristiano católico vete a un colegio público

que aquí hay que pagar con esta conducta los centros algunos centros concertados estos centros concertados de constatarse esta realidad no solo fracasaron en los objetivos educativos porque el objetivo educativo fundamental es la convivencia

al hacerlo vulneraron la ley porque la ley impide prohíbe criterios discriminatorios a la hora de admitir los alumnos por eso le pregunto señora

ante esto como reacciona usted qué va a hacer eskerrik asko celaá andrea

no crea señora que no reconozco que no considero la dificultad del empeño que le estamos pidiendo

pero es que se ha producido un incremento se ha producido un incremento de la concentración de inmigración en la escuela pública particularmente en la ciudad de vitoria

más difícil de tratar en los centros educativos puesto que como sabemos la población de vitoria es fundamentalmente de lengua distinta a la de la escuela es del magreb es africana se ha producido un incremento en los dos últimos cursos

que proporciona el propio departamento de educación por eso señora no solamente hay que trabajar como veníamos trabajando sino con mucha más intensidad y usted tiene que identificar y tiene que tener una conversación muy seria con las patronales de los centros concertados porque conductas de esta naturaleza

a este respecto y por nuestros decretos de la comunidad vasca que taxativamente prohíben criterios discriminatorios como de raza origen

renta por tanto con las correspondientes sanciones

si estas conductas se han producido hemos de hablar con las patronales hemos de introducir criterios con inspección
para que conozca eskerrik asko celaá andrea la situación grave

ese hecho pudiera tener relación con un articulo que hemos podido leer estos días en internet no sé si lo conoce pero según señala ese articulo y lo voy a leer literalmente el caso de samira es fruto de un experimento llevado a cabo por el sindicato stee eilas

en todo caso nosotros seguimos trabajando trabajamos para que todos los niños y niñas con independencia de su origen estudien y aprendan y convivan en los centros en condiciones de igualdad sin distinciones y con el respeto que todos y todas merecemos

con medidas específicas y además estamos trabajando en el análisis y definición de medidas concretas que den respuesta a las diversas reclamaciones de la sociedad del parlamento y del consejo escolar con el fin de dar solución a una situación compleja que se viene produciendo desde hace años

entre las medidas que se están barajando que estamos trabajando podemos destacar las siguientes

reserva del diez por ciento de incremento que permite el decreto de admisión para las necesidades de la administración entre las cuales se prioriza la inclusión y la cohesión social mayor coordinación interinstitucional

impulso de todos los planes que tenemos en marcha de atención al alumnado inmigrante

de diversidad de refuerzo lingüístico etcétera como defensa de la línea estratégica de escuela inclusiva recogida en el plan heziberri dos mil veinte

tampoco se trata de un problema entre centros concertados y públicos es un tema que nos preocupa y en el que venimos trabajando seriamente una situación de profunda raíz social en la que hay que trabajar con ideas específicas en el ámbito educativo

egun on lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok ayer este parlamento vasco constató

reiterado de los compromisos del gobierno vasco en relación al calendario legislativo a día de hoy cinco proyectos de ley de los veintinueve proyectos de ley que iban en el calendario legislativo por mucho que el gobierno y el grupo que apoya al gobierno quiera dar piruetas y enredarnos en conceptos básicos

muy claros en cuanto es la actividad legislativa y también la actividad ejecutiva del gobierno que también comprende el impulso de proyectos de ley

y desde luego sintomático de dónde están las prioridades de este gobierno nos decía recientemente el consejero toña que en relación a la ley vasca de empleo se renunciaba porque

imposible en lo que quedaba de legislatura que el borrador inicial no era adecuado desde luego señor toña hay que agradecerle la sinceridad de sus palabras

en evidencia y en el lugar al que corresponde al gobierno al que pertenece pero hay otro incumplimiento bastante evidente que es la ley de cooperativas que ha ido modificándose la fecha en las adaptaciones del calendario legislativo pero la primera fecha prevista

ese proyecto de ley todavía no está a la ley vasca de empleo ni está ni se le espera pero esta todavía desde luego no sabemos si la vamos a poder esperar en una comunidad autónoma pionera en materia de cooperativismo cuando todos somos conscientes y este gobierno debería de serlo

en nuestra economía y la necesidad obviamente de impulsarlo y reforzarlo por eso le preguntamos señor toña

cuáles son las razones que han llevado a este gobierno a renunciar y a legislar sobre temas clave para la consolidación de la recuperación económica en euskadi como el impulso de la creación de empleo

edo enpleguaren sustapena moduko gai delikatuei en el departamento de empleo y políticas sociales no hemos renunciado a trabajar para que podamos tener un texto base como proyecto de ley no pero siendo fieles a la realidad

reconocí y reconozco que no tengo tiempo material para que este texto llegue a este parlamento antes de que finalice la legislatura

nuestras propias limitaciones es un ejercicio

y debemos aceptarlo como un valor de todos con todos creo que esto ayuda a mejorar nuestras relaciones políticas y personales

el texto de empleo del sistema vasco de empleo a las normativas superiores la última la ley estatal de empleo de veintitrés de octubre del año pasado hace cuatro meses y de tener un texto en el que todas las partes se encuentren cómodas y son muchas

del calendario legislativo desde la perspectiva realista de la tramitación que antes he hecho referencia pero quiero dejar claro que no hemos desistido en su elaboración

una gestación reflexionada con todos los agentes y consensuada de un sistema vasco de empleo estará listo para su tramitación

en lo que respecta a la economía social como supongo que conoce el anteproyecto de ley de cooperativas de euskadi se encuentra en estos momentos finalizando su tramitación interna quedando únicamente pendiente el dictamen de la cojua para su aprobación por el consejo de gobierno

a este parlamento para su tramitación debate y aprobación eskerrik asko toña jauna garrido andrea zurea da hitza

que no le daba tiempo por lo tanto este gobierno cuando hace la previsión del cumplimiento de su calendario legislativo

en cuanto al proyecto de ley de cooperativas es que la previsión en el calendario legislativo hablaba del primer semestre de dos mil catorce

en el primer semestre de dos mil dieciséis dos años de retraso para traer el proyecto de ley de cooperativas a este parlamento yo creo que los datos

en la gestión legislativa renunciando a estos proyectos de ley en temas clave para afianzar la consolidación de la recuperación económica en euskadi y eso que la consolidación de la recuperación económica y el impulso del empleo era uno de los retos que se marcaba el lehendakari para esta legislatura

que esas sí que estaban en su mano para consolidar esa recuperación económica en euskadi y no vivir simplemente de las rentas los que hacen otros gobiernos desde luego

a la práctica esto es una nueva muestra de un gobierno que está al margen de la realidad un gobierno más centrado en la propaganda en el autobombo

en el escapismo o simplemente conformarse con estar más que pasarse a la acción y simplemente que se deja guiar por el curso de los acontecimientos en definitiva un gobierno

y que demuestra una clara falta de ambición al no ser capaz de cumplir sus compromisos

señora garrido he dicho que priorizamos el consenso leyes sin consenso son siempre inestables y solo le pongo como ejemplo la ley de educación

y políticas sociales ni este gobierno han renunciado a trabajar en la elaboración de una ley vasca de empleo ni en dar forma a un sistema vasco de empleo ni en traer a este parlamento

los cambios continuos en la legislación estatal que nos obligan queramos o no en esta materia también han complejizado ciertamente su elaboración beraz

sí gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor lehendakari su partido el partido nacionalista vasco ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja

separada de la nacional en fases sucesivas que incluiría el traspaso de la gestión económica y posteriormente la creación de un sistema específico propio de protección en euskadi y navarra sistema habilitado no solo para recaudar las cotizaciones y pagar las pensiones y otras prestaciones sociales sino incluso regido por legislación independiente de la nacional la reivindicación nacionalista se hace pública en un momento relevante para la política española y la gobernabilidad del país ahora que el líder socialista pedro sánchez pretende al parecer ser investido presidente de españa

y por tanto pudiera servir como ha demostrado la historia para perjudicar la unidad del estado y a la mayoría de los ciudadanos españoles y para avanzar en la fragmentación y la ruptura de españa a cambio de avances en el autogobierno vasco y sobre todo en avances en sus propios intereses políticos

es esencial denunciar tales intenciones derecho a decidir nuevo estatus político para euskadi nación política seguridad social propia

pondrá encima de la mesa política y de negociación antes o después y dado que el resultado de dichas negociaciones para formar gobierno nos afectará

es preciso preguntar por ello según los expertos el déficit estimado para las cuentas de la seguridad social en euskadi

durante años y no reduciría el déficit según la mayoría de estudios el desajuste entre ingresos y gastos del sistema

crecerá en el futuro es decir la propuesta planteada por el partido nacionalista vasco perjudicaría gravemente a los ciudadanos vascos

si es consciente del riesgo que supone hacer una semejante una propuesta nacionalista para contentar a los nacionalistas pero que en el fondo perjudicaría a todos al conjunto de los ciudadanos vascos nacionalistas
y no nacionalistas eskerrik asko

jaun andreok egun on menos mal señor maneiro que el partido nacionalista vasco ha pasado de ser irrelevante a que puede ser decisivo

y en todo caso también en la relación con el gobierno español que sea la agenda vasca

de los temas aprobados en el parlamento señor maneiro y yo como lehendakari lo que defiendo es la posición del informe

remitido por el gobierno vasco a la ponencia de autogobierno

en este informe defendemos asumir la gestión del régimen económico de la seguridad social dentro de su carácter unitario y de respeto al principio de solidaridad

le recuerdo que el estatuto es ley orgánica aprobada por las cortes generales y refrendada por la ciudadanía hace treinta y seis años

dice que corresponde a esta comunidad la gestión del régimen económico de la seguridad social quiero subrayar que la posición que defiendo no es solo del gobierno sino del propio parlamento vasco

con soporte legal y respaldo ciudadano pleno es una competencia irrenunciable para euskadi y yo sinceramente no veo ningún riesgo en que las instituciones vascas gestionemos la seguridad social

y a las pruebas me remito la gestión pública de sanidad de educación o protección social en euskadi no ha supuesto ningún riesgo para nada ni nadie

nacionalista no es la agenda vasca y habla además de un informe de parte no de la mayoría de los informes que se han planteado en los últimos tiempos

no estamos hablando de la gestión del régimen económico de la seguridad social

social propia y diferenciada del resto de españa es por esto por lo que yo le he preguntado y por lo tanto lo que nosotros defendemos es el mantenimiento de la caja

para defender el equilibrio para defender la solidaridad y para defender la fortaleza del propio sistema no nos interesa fraccionar el estado sino fortalecer la unidad e incluso ampliar esa unidad de hecho yo pienso que el futuro debería ser una seguridad social

sumar sumar más cotizantes sumar más ciudadanos eso es lo que nos interesa a todos evidentemente es imposible a ustedes convencerles de nada de esto yo lo que pido al partido popular y al partido socialista es que en los próximos meses en los próximos años no ceda al chantaje

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro la agenda vasca en cuanto a lo que pueda ser el planteamiento del partido nacionalista vasco en relación
a las negociaciones en su caso para la conformación del gobierno de españa está basado en lo que a autogobierno se refiere

en todo caso informe de parte el que el gobierno vasco haya entregado a petición del parlamento del pasado quince de septiembre

y con toda lógica se planteará al siguiente vamos a propiciar un acuerdo porque no nos resignamos

incumplido según lo que dice el estatuto y también según lo que dice por lo tanto la disposición transitoria quinta

yo soy consciente de las dificultades que atraviesa el mantenimiento de la seguridad social ahora bien lo que no llego a entender es que se hable de riesgo en referencia a euskadi y no se hable de riesgo en referencia a españa en la situación

la garantía individual de las personas es mayor si se gestionan desde euskadi aquí cotizan sesenta y cuatro personas de cada cien y en españa solo cincuenta y siete

para pensiones mañana la seguridad social vasca es una garantía para las pensiones y el autogobierno es sinónimo de bienestar y calidad de vida por lo tanto en cualquier caso las instituciones vascas estamos dispuestas a asumir la gestión del régimen económico de la seguridad social así se pactó en el estatuto se refrendó por la ciudadanía
y lo viene reclamando el parlamento vasco eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

señor lehendakari comencemos haciendo un pequeño resumen de lo ocurrido empezando por lo más reciente la autoridad vasca de la competencia ha emitido una dura resolución en la que considera que siete empresas de catering han actuado como un cártel

los precios de los concursos para el suministro de los menús de los comedores escolares de la red pública del gobierno vasco la sanción la más alta de la historia de este

de euros ha quedado demostrado que los precios eran más elevados que los ofertados por estas mismas empresas para comedores de otras redes escolares hasta un treinta por ciento y que había un reparto de los lotes se da el caso de que un grupo empresarial controla casi el sesenta por ciento de las adjudicaciones de los comedores escolares de la red pública

durante al menos una década y que no puede garantizar que esas prácticas contrarias a la competencia no comenzaran antes en todo este tiempo ningún departamento de educación del gobierno vasco ha hecho nada para corregir todo esto para que pueda ser

y evidentemente denunciado la consejera la consejera

es grave porque se beneficiaron al máximo del precio de licitación durante diez años

de la convocatoria de aprobar las bases de desarrollar y adjudicar los concursos diga que es grave que se haya demostrado la actuación de un cártel que ha estado inflando manipulando todo el proceso repartiéndose el mercado y aprovechándose de la falta de control como mínimo de la propia administración que ella dirige

salvo que el responsable sea un servidor señora consejera alguien tendrá que ser el responsable de esto y usted es la responsable de educación del gobierno vasco le digo esto porque está diciendo que no con la cabeza y evidentemente algún responsable habrá señalaba también usted señora consejera que las familias no se han visto

que viene a ser el sesenta y cinco por ciento del precio total del menú sin embargo la propia autoridad vasca de la competencia señala que es difícilmente sostenible que si ha habido un sobreprecio no haya repercutido en parte en las familias esto es totalmente lógico ya que si el menú hubiera sido más barato

que se cobra a las familias hasta un treinta por ciento menos y hubiera tenido que pagar muchos miles de euros menos en las ayudas que otorga

recursos es muy grave que el gobierno haya pagado unos doscientos millónes más durante esta década que ha investigado la autoridad vasca de la competencia a lo que tendríamos que sumar varios millónes más que se podría haber ahorrado

en esas becas de comedor la autoridad vasca de la competencia también señala que no hemos considerado acreditado que el gobierno tenga una responsabilidad directa en la existencia del cártel esto también lo dice la autoridad vasca de la competencia no ha quedado

del gobierno pero que no se haya conseguido acreditar tal hecho

no significa que no haya sido directamente responsable en todo caso en todo caso en todo caso es posible es posible que haya que hacer desde este parlamento para investigar a fondo estos hechos supongo señor lehendakari que en fin ustedes no tendrán ningún tipo de miedo a que

durante todos estos años por si estamos hablando de falta de control de pérdida de dinero público de derroche o si estamos hablando de algo más quién sabe

y sospechas las hay graves sospechas desde el momento en que se impuso un sistema de acreditación de las empresas suministradoras previo a poder concursar

sin los certificados necesarios para ser empresa homologadora y un solo funcionario sin preparación específica en el asunto las sospechas son más que fundadas pero lo grave es que este hecho venía siendo reiteradamente denunciado desde hace años por otras empresas

porque ni siquiera eran homologadas y el gobierno hizo siempre oídos sordos a esas denuncias el gobierno miro para otro lado no quiso investigar no atendió esas quejas como se debía las sospechas de que aquí ha habido una gran estafa están más

y no precisamente ahora que han sido ratificadas por la resolución de la autoridad vasca de la competencia las sospechas eran anteriores y ahora se han visto ratificadas

vienen de años atrás y el gobierno no ha movido un dedo para evitarlo

este problema en el tiempo no se ha hecho nada durante largos años para evitar lo que efectivamente ha aflorado la propia autoridad vasca de la competencia de cualquier forma más allá de las sospechas que cada uno podamos tener lo que hoy queremos saber y nos gustaría conocerlo por boca del lehendakari ya que la gravedad del asunto

consejera es qué va a hacer el gobierno para evitar que el cártel de los comedores escolares siga funcionando con el consiguiente perjuicio económico tanto para la administración

de forma inmediata para que el próximo curso no ocurra lo que viene ocurriendo desde hace una década

para que de verdad se restablezca la competencia para que se abra

previo a los concursos si se van a seguir fijando lotes cerrados

y a qué se van a destinar esos dieciocho millónes de euros esa multa

a esas empresas en fin qué va a hacer el gobierno cómo va a reaccionar teniendo en cuenta que en los años anteriores no ha hecho demasiado sino más bien nada a parte de mirar para otro lado

a parte de sonreír cuando se le pregunta por estos hechos esto es lo que básicamente queremos saber hay más grupos que van a preguntar sobre esta cuestión es un escándalo que ha salido a la opinión pública y evidentemente el gobierno la consejera el lehendakari o quien sea tienen en fin la obligación

cómo va a reaccionar ante estos hechos qué se va a hacer cómo se va a actuar qué responsabilidades se van a asumir

una investigación más a fondo para esclarecer cualquier tipo de duda que pudiéramos tener gracias eskerrik asko maneiro jauna

muchas gracias señora presidenta
lehendakari señorías estamos ante un escándalo de enormes proporciones de millónarias proporciones yo brevemente en un minuto quiero acordarme de una persona la persona que trajo a este parlamento este asunto un empresario vasco

que acosado por un cáncer y cuando ya poco tenía que ganar vino a explicarnos exactamente lo que estaba pasando años viendo cómo se negaban a otras empresas a participar en esta contrata de comedores escolares

a decir oiga mire en el próximo concurso de los comedores escolares van a ganar los lotes estas empresas y con este precio en cada uno de los lotes y resulta que aquello era exactamente lo que pasó aquello que él dijo

ha fallecido y yo quiero recordar hoy aquí que estamos

un asunto de corrupción que afecta a la mayor contrata del departamento de educación del gobierno vasco

ya ha hablado luego no estamos ante sospechas estamos ya valorando hechos irregularidades que tienen su origen en el propio sistema de contratación que estableció el gobierno vasco

el tribunal de la competencia el tribunal de la competencia ha valorado los hechos que se denunciaron en un periodo de años concretos pero

nos vamos al año mil novecientos noventa y siete nos encontramos que desde mil novecientos noventa y siete señorías las mismas empresas se han llevado todos los contratos las mismas

años no solo los diez años de los que trata la denuncia

al precio máximo de licitación curiosamente ni a los técnicos que supervisaban el proceso siempre los mismos técnicos qué casualidad siempre los mismos técnicos desde mil novecientos noventa y siete oiga han cambiado los consejeros han cambiado los gobiernos

durante dieciocho años y siempre adjudicando a las mismas empresas

a ninguno de estos técnicos de la mesa de contratación llamó la atención

concurso tras concurso las mismas empresas y a precio máximo las que se llevaran las contratas qué curioso todo en este asunto señorías es atípico e irregular

del contrato público como les decía de mayor volumen del departamento de educación un proceso pensado desde el principio para el fraude en su fase inicial la validación de las empresas porque aquí se estipuló un modelo de contratación

se establece que una empresa privada una empresa privada señorías examinará y decidirá qué empresas pueden competir y presentarse a la contrata

la empresa encargada de valorar y decidir quién puede participar ha sido siempre elegida la misma durante dieciocho años laboratorios araba

laboratorios elegidos para filtrar este concurso durante dieciocho años casualmente siempre ganó el concurso previo

casualidad ha sido asesor privado laboratorios araba ha asesorado

de las empresas que se llevaban los contratos casualidad lo habitual

se comprobó que ni el técnico del gobierno vasco estaba acreditado al afecto ni la empresa

todo un escándalo de enormes proporciones casualmente laboratorios araba no estaba inscrito en el registro de empresas certificadoras autorizadas para auditar los sistemas de calidad

es la que elige el gobierno vasco durante dieciocho años para

las instalaciones para efectuar la homologación de las empresas el señor javier arrese técnico del gobierno vasco que resulta que

es el designado por el gobierno vasco para homologar y calificar a las empresas en relación con su calidad para

qué casualidad señorías los mismos lotes a las mismas empresas

pagaba un treinta por ciento más que el precio de mercado

una ikastola pagaba menos comprando doscientos menús que el gobierno vasco comprando noventa y cinco mil oiga y dieciocho años después

a nadie del gobierno vasco le sorprendía ni a los técnicos ni a la empresa

cuando empresas que habían intentado participar y se les cerraba la puerta lo venían denunciando desde el año dos mil cuatro concurso del dos mil siete dos mil once

dos mil once y seguimos así hasta el dos mil quince era público y notorio señorías que esto estaba ocurriendo y desde el gobierno vasco se miraba por otro lado a nadie le sorprendía al parecer efectivamente que pudiese estar

el mayor contrato no uno de los contratos del departamento de educación sino el mayor contrato del departamento sobre el que había sospechas y nadie se percataba de que se estaban llevando las mismas empresas oiga casualidad de las siete empresas que se lo llevan crudo tres pertenecen al mismo grupo tienen el mismo capital social grupo mondragón aquí

ha habido complicidad para beneficiar a empresas provocando un quebranto millónario a las arcas públicas señorías señor lehendakari y señora consejera se ha perjudicado el interés público señor erkoreka que vino el otro día a los medios a decir que no que esto a las familias ni al interés público no le había provocado no no el único perjudicado es el gobierno vasco debe ser que el dinero del gobierno vasco es suyo

para la sociedad vasca ni para las familias no no oiga el dinero del gobierno vasco de quién es

se ha estado tomando el pelo a todo el mundo porque se ha estado pagando más de doscientos millónes

más de ochocientos millónes de euros se han llevado crudo por encima y por sobrecosto más de doscientos millónes de euros de dinero público

de los centros públicos que llevan a sus hijos a esos comedores escolares porque por supuesto que en estos años de crisis donde se ha estado reclamando aquí rebajas en la tarifa de los comedores escolares

un treinta por ciento la tarifa que pagan las familias en los comedores escolares si se hubiese atendido a las sospechas que se habían puesto encima de la mesa desde hace años en este parlamento ha tenido que ser el tribunal de competencia el que les diga a ustedes que esto ya era un escándalo

dieciocho millónes de euros cuando se han estado metiendo al bolsillo doscientos y pico millónes de euros que no les correspondían

les ha salido muy barata la multa dieciocho millónes de euros seis millónes de euros a una de las empresas la más alta la más grande el año pasado con esto ganó más de ocho millónes de euros solo con esto en un año

que desde el gobierno se asuman responsabilidades eso es lo que nosotros entendemos una enorme operación de fraude

a empresas determinadas yo aquí ya no estoy para discutir si ha habido los intermediarios

si aquí ha habido corrupción de personas lo que ha habido es negligencia por parte del gobierno por acción o por omisión

alguien tendrá que velar por las contratas públicas alguien tendrá que velar

el gobierno los responsables del departamento tendrán que velar y yo estoy convencido estoy convencido de que se ha dejado hacer estoy convencido de que este proceso no se habría podido materializar

o consentimiento de responsables públicos es imposible que durante dieciocho años las mismas empresas se lleven los principales contratos del departamento de educación a precio máximo

sin que nadie diga nada es imposible que esto se haya producido

de acción omisión sin que se haya posibilitado esta práctica desde el propio departamento de educación es por eso que se hace imprescindible

qué va a reclamar a las empresas qué va hacer a partir de ahora con los responsables de todo este procedimiento desde hace

la actuación de las empresas del procedimiento contractual

y la segunda este gobierno ha sido el primero y el único que ha modificado el sistema de contratación que se instauró

efectivamente advertimos un margen de mejora y lo acometimos consecuencia de ello

que sin duda perjudicaba al interés general por lo que en relación a las medidas que va a tomar el gobierno vasco creo que está muy claro

ha actuado ya había tomado medidas previamente a la resolución de la autoridad vasca de la competencia como señalaba entiendo que se ha de explicar el tema nuestra sociedad merece conocer con claridad lo ocurrido para ello hemos de remontarnos al año dos mil en el que mediante orden del entonces consejero de educación

dicha ordenación obedecía a dar respuesta a un contexto marcadopor la aparición de los denominados servicios complementarios servicios que en buena medida se gestionaban a través de la

y una heterogeneidad enormes que existían diferencias en los contratos del personal laboral de las personas que estaban encargándose del servicio de los costes de funcionamiento de las cuotas de la propia prestación de servicio etcétera por tanto se partía de una prestación de servicios de comedor cuya casuística estaba generando algunas situaciones y consecuencias

entonces la propia administración advirtió la necesidad de implantar un sistema de gestión de comedores que resultara más igualitario equitativo y homogéneo

de un procedimiento de gestión de comedores unitario y que garantizara la igualdad en su gestión esta forma de gestión la actualmente vigente pivota sobre la necesidad de garantizar la seguridad y la salud de nuestros niños y niñas

en ningún caso se puede hablar de fracaso prueba de ello es que no hay casos de problemas derivados de servicios de comedor

zein zailtasun dituen neurri honetako proiektu bat martxan jartzeak en lo que a la contratación pública de comedores escolares se refiere

que han sido objeto de investigación por parte de la autoridad vasca de la competencia dicha entidad ha contado desde el primer momento con la colaboración de nuestro departamento en cuanto primer perjudicado ante una posible práctica contraria a la competencia como decía se ha trasladado un mensaje erróneo

al imputar al gobierno una práctica que según la autoridad vasca de la competencia

obviamente un actuar de las empresas el gobierno vasco el actual

han procedido a la contratación de los servicios necesarios para la prestación del servicio de comedor en centros públicos con absoluto respeto a los principios que han de regir la contratación pública y que se ven avalados por los por los preceptivos informes jurídicos y técnicos como bien conocen sus señorías

exige toda una serie de trámites y garantías de legalidad cuyo cumplimiento los poderes públicos hemos de ser y este gobierno lo es del todo escrupuloso

el departamento que dirijo acometió ya en dos mil catorce la elaboración de unos nuevos pliegos que regularan

esto es la legislatura anterior se plantea por tanto a la primera ocasión un nuevo procedimiento de contratación que modifica sustancialmente los anteriores

esta nueva forma de contratación fue anunciada por mí misma ante este parlamento en sesión de control celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil catorce

el procedimiento garantiza los principios de libertad de acceso a las licitaciones publicidad y transparencia en los procedimientos

la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos

y la elección de la oferta más ventajosa sin que ello supusiera menoscabo alguno de la calidad de la prestación de servicio

nuestro procedimiento y sus características pivotan sobre la idea de garantía de la prestación del servicio de comedores a nuestros alumnos y alumnas con las condiciones de mayor calidad

y sí señores esa es nuestra obsesión ninguna otra pero además se persigue posibilitar una mayor participación de las empresas y por supuesto un mayor reparto en la adjudicación

a tal fin y como modificaciones más significativas respecto a los contratos anteriores podemos subrayar el incremento en el número de lotes de licitación de diez a dieciocho lotes de diferentes volúmenes para facilitar la participación de diferentes empresas desde el punto de vista de su capacidad

se obliga a que en cada lote haya un mínimo de dos ofertas que concurran al mismo de no ser así el lote queda desierto y ha de volver a licitarse como ha ocurrido en un caso en este caso tiene razón el señor lazarobaster ha habido una prórroga de contrato

no puede ser de otra manera en la calificación de la solvencia técnica así mismo se introducen mayores garantías

en este procedimiento todas las empresas que se presentaron a la licitación pasaron la primera fase incluida aibak fase que se refiere a la evaluación de la solvencia

y la necesidad de la competencia entre las posibles licitadoras jakitun gara prozesu konplexua dela eta hamaika aspektu eta interes gurutzatzen direla bertan

tal es así que el curso dos mil catorce dos mil quince casi cuarenta y cinco mil alumnos de la escuela pública

no tuvieron que hacer abono alguno en este concepto hubo veintiocho punto cuatro millónes de becas en la red pública

del componente de becas de comedores para ir finalizando este gobierno y entiendo que los anteriores

con la debida calidad y seguridad alimentaria mediante un proceso de contratación que se rige por los principios de publicidad transparencia y concurrencia y vuelvo a aclarar

y vuelvo a repetir espero que después de esta intervención les haya quedado

sí gracias presidenta señora consejera hemos sido varios grupos distintos los que hemos planteado esta misma cuestión

la preocupación que nos provoca este asunto y con el objetivo de que el gobierno haga todo lo posible para evitar estas prácticas en el futuro y para que evidentemente se tengan que asumir todas las responsabilidades que correspondan en relación a lo

estas prácticas fraudulentas que al fin y al cabo este es el objetivo de los grupos que hemos planteado estas interpelaciones en fin parece evidente que este gobierno pero no solamente este gobierno sino también los gobiernos anteriores erraron

en su forma de proceder y permitieron por acción o por omisión que se llevará a cabo esta estafa y evidentemente de esto no somos responsables los grupos parlamentarios sino principalmente el gobierno y en concreto los departamentos de educación de este gobierno y de los gobierno anteriores porque como digo en fin erraron en su forma de proceder

por acción o por omisión esta estafa estamos hablando de trato de favor que recibieron determinadas empresas estamos hablando de

de determinados elementos de la administración estamos hablando de negligencias graves

inacción en la acción de control por parte del gobierno vasco largos años durante los cuales se produjeron

estas formas de proceder estamos hablando de quebranto de dinero público de quebranto de dinero público y estamos hablando de miles de miles de familias que se han visto perjudicadas como consecuencia de estas prácticas fraudulentas

asunción de responsabilidades y cambios cambios profundos no cosméticosy completos no insuficientes en la forma

en fin es lo menos que se le podía exigir el asunto es qué han hecho antes durante largos años

que no hicieron nada y que da la sensación que usted ustedes varios gobiernos

de hecho lo que hicieron fue permitir esta estafacontinuada en el tiempo

este gobierno debería solicitar en los tribunales una indemnización por daños y perjuicios a estas empresas estamos hablando de un quebranto de dinero público

y por lo tanto esto es una de las primeras cosas que debería hacer este gobierno para saldar este fraude mayúsculo una práctica ilegal

pasó desapercibida a varios departamentos de varios gobiernos en manos de varios partidos políticos diferentes y esto ciertamente llama la atención que estos hechos pasaran desapercibidos no solamente para este departamento sino departamentos anteriores evidentemente ahí también habrá algún tipo de responsabilidad política en lo que se refiere a este mismo gobierno y como digo a gobiernos anteriores el gobierno se escuda en que ha cambiado el sistema de adjudicación pero lo cierto es que este supuesto cambio no cambió en lo sustancial

se cambió para que todo siguiera básicamente igual y se siguió permitiendo la estafa y la existencia del cártel de empresas que concertaban precios

en lo sustancial este cambio que usted vende como cambio total que limpiaba supuestamente las prácticas anteriores realmente no ha sido tal

esta forma de proceder en todo caso más allá de que se pueda conformar una comisión de investigación en este parlamento nosotros vamos a proponer una moción una moción para pedir al gobierno de modifique de cara al próximo curso el sistema de adjudicación

escolares en la red pública de enseñanza de tal forma que se evite el fraude vamos a pedir al gobierno que se respete también la decisión de las comunidades escolares

que quieran establecer en su centro vamos también a pedir al gobierno que la multa de dieciocho millónes de euros impuesta por la autoridad vasca de la competencia

directamente en los comedores de los colegios de la red pública y vamos a pedir también que se investigue a las empresas adjudicatarias a fondo

señora consejera señor lehendakari usted dice que en cuanto vieron esto procedieron a cambiar el modelo y el sistema mire

que solo nos dice si ha habido concertación de empresas pero es que a usted le pedimos responsabilidades sobre todo lo que ha pasado en el procedimiento se lo he contado y usted lo conoce y no nos dice nada de por qué estuvo pasando eso durante dieciocho años por qué el mismo laboratorio por qué el mismo técnico

eran siempre los responsables de tomar las decisiones por qué se permitió eso señora consejera y mire usted

porque usted dice no ya hemos tomado medidas hemos cambiado el sistema

usted nos toma por tontos porque cree que no nos miramos los papeles y nos hemos mirado lo que han hecho ustedes último contrato dos mil once porque aquí esto señores de bildu esto no es año por año señores de upyd esto no es para el curso que viene lo cambiamos no no

dos años más dos de prórroga la última del dos mil once y ustedes

diciendo que había que cambiarlo y ustedes el modelo que han hecho en el dos mil quince no es para solucionar el problema han hecho un sistema a medida para seguir beneficiando a las mismas empresas

en el sistema que ustedes han cambiado sabe quién se ha llevado los dieciocho lotes han cambiado de diez lotes

las mismas seis empresas multadas por el tribunal de la competencia ni una distinta ni una sola distinta las mismas seis empresas y ustedes qué han hecho vestir el asunto para que parezca más razonable

y ustedes han cambiado las condiciones para que aunque me pongan a mí

no puedo filtrar porque han cambiado las condiciones a medida de esas empresas para que aunque hayan puesto ustedes ahora aenor para que les dé a ustedes apariencia de solvencia

y aenor no ha podido hacer otra cosa que cumplir con las condiciones que ustedes han puesto a medida para que sigan siendo las mismas seis empresas las que se lo lleven crudo y saben cómo se lo han llevado esta vez

en este modelo a sabiendas de lo que estaba pasando pues de los dieciocho lotes la mitad a precio máximo y sabe lo que ha pasado usted que dice que ha traído un nuevo modelo

para poder participar hay que tener una facturación millónaria ninguna pequeña y mediana empresa vasca puede participar pero ninguna de las grandes de las comunidades autónomas vecinas tampoco vienen aquí

ninguna empresa grande viene y ustedes han cerrado la puerta a las pequeñas y medianas empresas vascas sabe por qué porque ustedes dicen

se exige que participen dos empresas distintas y sabe en cuántos lotes han participado las mismas empresas en cinco de los lotes han participado

empresas con el mismo capital social eso no es libre concurrencia

y en los lotes participaban dos pero son la misma son empresas del mismo propietario eso es simplemente para disimular

participación de dos empresas ha participado la misma de siempre auzolan lo han dejado desierto y a que no saben a quién han decidido

o sea ustedes en lo que dejan desierto permiten que lo siga haciendo la de antes

permiten que los nuevos lotes participen empresas que son del mismo propietario y a precios máximos ustedes siguen permitiendo que las mismas empresas multadas

ustedes han decidido organizar un nuevo sistema que parezca más razonable para seguir perpetuando

nosotros creemos que hay elementos suficientes para ir a la fiscalía no ya a la autoridad de la competencia para ir a la fiscalía

ustedes a la fiscalía anticorrupción si no lo haremos nosotros hay elementos razonables para ir a la fiscalía

ha habido connivencia necesaria del propio departamento y ustedes tendrán que decidir de quién ha sido si de técnicos o de políticos

este fraude millónario durante dieciocho años sin la connivencia de la propia administración y ustedes tendrán que delimitar

hasta los responsables políticos de cada uno de los gobiernos a ustedes que han tenido la oportunidad de cambiar el sistema
y lo han perpetuado para que se los mismos eskerrik asko oyarzabal jauna jaurlaritzaren ordezkaria uriarte andrea zurea da hitza

comparto plenamente el juicio sobre la gravedad de lo acaecido esto es el perjuicio causado a la administración

en ningún caso se puede hablar delfracaso del actual sistema de comedores escolares ez du porrot egin este gobierno escucha estamos trabajando en la puesta en marcha de un proyecto piloto junto con las

y es una tarea muy compleja que servirá para evaluar otras formas de gestión por lo tanto seguimos trabajando este gobierno es quien ha modificado el sistema de contratación el procedimiento garantiza los principios de libertad de acceso a las licitaciones

se persigue y se ha conseguido posibilitar una mayor participación de las empresas y por supuesto un mayor reparto en la adjudicación el nuevo procedimiento por lo tanto ha garantizado la concurrencia y la necesidad de la competencia entre las posibles licitadoras ahora es necesario la concurrencia de al menos dos empresas en cada uno de los lotes para proceder
a la adjudicación oyarzabal jauna mesedez zure txanda pasa da eta lópez de ocariz berdin es decir este gobierno ya ha actuado no sé si usted se puesto a pensar por qué no se presenta más empresas porque no se han presentado más empresas

nahikoa da voy terminando

en el que se entrelazan múltiples aspectos e intereses usted ha citado en relación al técnico

en estos dieciocho años usted es lo que ha dicho

al que usted alude y que ha dado incluso su nombre es imposible imputarle una responsabilidad sobre los diez años anteriores porque tiene contrato desde el año dos mil diez por lo tanto es imposible imputarle desde mil novecientos noventa y siete usted ha dicho el mismo técnico

además todas las modificaciones que se han incluido fueron ya presentadas en cierto modo ante la comisión de educación

y como ustedes saben hasta ahora era un laboratorio que también usted lo ha citado el encargado de homologar sin embargo

con la participación de un auditor independiente del sector una persona fuera de la comunidad autónoma del país vasco también vamos a cuestionarle su trabajo además se han endurecido las condiciones para llevar a cabo dicha valoración siendo necesario valorar la gestión técnica de las empresas comprobar que tenga utensilios necesarios

y si estamos hablando también de tamaños tendremos que garantizar el servicio no podremos decir que cualquier empresa puede llevar este volumen de negocio

a ver en este proceso se han dicho muchas cosas así por ejemplo hace escasamente un mes y refiriéndose al nuevo contrato una central sindical me acusó de y cito textualmente

la misma central sindical este lunes me hace responsable última del encarecimiento del servicio

incomprensible señor oyarzabal por su parte también hay comentarios que no se pueden hacer ni siquiera

este gobierno del pnv ha sido el que ha realizado los necesarios cambios para evitar que este tipo de situaciones se puedan repetir tenemos que irnos muy atrás en el tiempo a la segundo legislatura

en todo este tiempo han sido consejeros y consejeras de pse y de eusko alkartasuna quienes han ostentado estas responsabilidades y estoy segura

este gobierno no cuestiona el trabajo anterior la legalidad de dichas actuaciones conocedores como somos de lo escrito de las normas que debemos tener en cuenta en la contratación de servicios informes técnicos asesoramientos jurídicos etcétera como ejemplo el último acuerdo

de recursos contractuales como ante los tribunales en ambos casos se desestimó la reclamación de la empresa

debe quedar claro que este gobierno es el que ha colaborado en todo momento con la autoridad vasca de la competencia que ya he dicho anteriormente y ha sido respetuoso con la exigencia de esta en lo relativo al deber de guardar secreto

en la que decía literalmente que todos los que formen parte en la tramitación de los expedientes sancionadores o que conozcan tales expedientes por razón de su profesión cargo o incluso intervención como parte deberán guardar secreto sobre los hechos de que haya podido tener conocimiento

el incumplimiento de este deber puede llevar aparejada responsabilidad penal civil y administrativa señor oyarzabal esto no se parece en nada a los casos de corrupción de los ere de andalucía ni al caso pujol como usted ha dicho pero tampoco se parece al caso palma arena al caso bárcenas al caso camps al caso gürtel al caso fabra

señor maneiro le parece curioso el análisis que esta consejera hace de la situación porque usted

espero que después de la intervención le haya quedado claro cuál es la responsabilidad de cada uno y vuelvo a aclarar la autoridad vasca a la competencia ha resuelto sobre las posibles prácticas contrarias a la libre competencia de las empresas en perjuicio

casi treinta años después de aquel veredicto rotundo de la ciudadanía vasca en contra de la otan diría que aquella decisión se adelantó a su tiempo ahora podemos comprobar que ni tan siquiera aquellas tres condiciones que se vinculaban a la entrada del reino de españa en la otan

y hoy en día sabemos que está incorporada tiene una representación permanente en la otan

la puesta a disposición de medios y capacidades la participación en operaciones de la alianza

sumisamente esa misión en operativos bélicos de agresión perpetrados hoy en día por la otan según la segunda condición se prohibiría instalar almacenar o introducir armamento

y según todos los indicios también esto se ha incumplido transportando y almacenando armas nucleares en puertos y bases militares del estado si bien este extremo debido a la situación de opacidad todavía casi casi no se puede verificar la tercera de las condiciones hablaba de producir una reducción progresiva de la presencia militar

se ha cumplido por el contrario se han ampliado la base de morón se ha impuesto en la derrota un

abierto otras nuevas bases ahora la otan

nuevos terrenos en los que intervenir sea en la guerra contra ese difuso terrorismo internacional sea enredada en una escalada armamentística con rusia o china

podemos considerar es todo el mundo no sé si se ha reeditado otra vez la guerra fría o si ya estamos de pleno en una nueva guerra mundial deslocalizada pero es que consideramos que el problema es

esa otan intervencionista que vulnera la legislación internacional con su ingerencia en terceros estados

esa otan belicista militarista imperialista

en pos de esos principios de la carta de naciones unidas en especial el principio de fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos y tomar medidas adecuadas para fortalecer universal esa otan que en vez de defender agrede que en vez de evitar nuevas guerras las provoca y nosotros este pequeño pueblo que la repudió nos vemos encadenados encadenadas a sus designios o a sus caprichos a decisiones en las que no podemos participar euskal herriko lurraldean ere ikusi dugu

reconozco señor arzuaga que siento un profundo respeto por cada ocasión en que la sociedad vasca

democráticamente su voluntad y hace treinta años en el referéndum sobre la permanencia del estado español en la otan así lo hizo usted me interpela sobre lo que está dispuesto a hacer hoy el gobierno vasco para hacer cumplir en la práctica lo que la sociedad vasca votó

y lo quiero recordar de circunscripción estatal para la permanencia o salida de españa de una organización como la otan en la que el gobierno vasco no tiene

tengo que decir por lo tanto que desde este punto de vista práctico por el que usted demanda resulta oportuno recordar esta obviedad esta cuestión es

es importante partir de esta consideración para no incurrir en un juego discursivo y dialéctico demagógico que todo lo soporta

estas tres décadas han representado un cambio radical en esta materia no solo en euskadi sino también en el orden y las relaciones internacionales han pasado treinta años

ni el mundo de hoy es el mismo que el de mil novecientos ochenta y seis y lo más importante quizás es que ni siquiera la otan es la misma organización hoy

en noviembre de mil novecientos ochenta y nueve usted plantea esta interpelación permítame la consideración

pero también creo que adelantándose a un debate que no se ha planteado en ningún terreno en todo caso es legítimo y me parece

no se ha planteado desde luego en el marco político tampoco en el institucional y me atrevo a decir que esta es una cuestión que tampoco forma parte por lo menos hasta el momento del debate social estos últimos años no se ha planteado la cuestión de la existencia o no de la otan la pertenencia o no a esta organización desde luego en euskadi

y tampoco en nuestro entorno es más cuando se ha producido este debate se

en determinados conflictos internacionales me refiero por ejemplo al caso de la antigua

en libia en dos mil once o más recientemente en ucrania o en el caso de siria egoera berria da beraz eta duela hiru hamarkadako espiritu hura eguneratzea dagokigu

el escenario ha cambiado y vivimos en un nuevo mundo más abierto y global estas nuevas circunstancias nos obligan a preguntarnos sobre

actual de aquella expresión de la voluntad de la sociedad vasca formulada en mil novecientos ochenta y seis nos corresponde realizar una interpretación no arbitraria de su significado y la pregunta es cómo interpretar hoy aquella expresión de voluntad popular de hace treinta años hacerlo conforme a la realidad social

desde mi punto de vista aquel hecho tiene hoy un significado fundamental la sociedad vasca se identificó y se sigue identificando con soluciones no bélicas con las vías diplomáticas y de diálogo nos hemos posicionado claramente en contra de la guerra el terrorismo y la violencia tal y como se pudo constatar

apostamos por europa y por una política europea de defensa y de seguridad común vamos a seguir utilizando los foros en que tenemos capacidad de influencia

del derecho internacional de los derechos humanos y el diálogo multilateral erreferendumetik hogeita hamar urte pasa dira eta galdera da beraz

de un cambio radical en la propia otan también y ciertamente

toma más como papel mojado la legislación internacional la legislación internacional humanitaria cada vez hay intervenciones de la otan

más laxos intervenciones que vuelvo a decir nos encadena a nosotros como pueblo son decisiones en las que no participamos pero que nos afectan directamente estamos sometidos

a la propia actuación de la otan como meros en cierta manera no sé si decir no protagonistas pero sí al menos

de la otan porque generan un impacto en nuestra sociedad y precisamente ese impacto social era el que creemos que tenemos que traer también a este parlamento

me habla usted de la circunscripción en la que se dio aquella decisión circunscripción española pero yo creo que

en este país que era tomar una decisión en un sentido bien concreto

en mi primera intervención incluso con países que anteriormente pertenecían al pacto de varsovia

en la referencia a lo que pudo ser un resultado

consultivo no un referéndum efectivo del cual cualquier responsable de una circunscripción afectada pudiera tener algún tipo de acción que ejercer yo defiendo una posición basada en valores para nuestro país el gobierno vasco va a seguir trabajando con la sociedad

la justicia y la igualdad un cambio cultural que asiente la convivencia no veo en ese sentido diferencia en lo que usted manifestaba también como compromiso de además mediante nuestra acción exterior y muy conscientes de la modestia de nuestra presencia y representación apoyamos políticas de convivencia internacional basadas en el derecho internacional humanitario y los derechos humanos

y cooperación al desarrollo espero que esto también pueda ser compartido con eh bildu y en situaciones de conflicto internacional rechazamos el unilateralismo

con alternativas enmarcadas en la legalidad internacional y que cuenten con el respeto de naciones y esto es lo fundamental en nuestro planteamiento la vocación pacifista manifestada de forma clara y reiterada por la sociedad vasca nos lleva

práctica y de solidaridad con las personas también refugiadas somos críticos con la política europea en este sentido y apostamos firmemente por una política de asilo y solidaridad el doce de marzo de dos mil dieciséis

tenemos una buena ocasión para reflexionar para contribuir a actualizar los valores de justicia y convivencia pacífica interna e internacional que se encuentra en el fondo de la sociedad vasca expresada aquel día y reiterada desde entonces

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari la interpelación que le hacemos no tiene nada que ver con la otan

es un tema que está ahora de actualidad por varios motivos quizás el último haya sido la aprobación no sé si doctrinal o no como decía el señor erkoreka del sistema vasco de pensiones

es otro de los temas que este gobierno su gobierno está planteando como negociación con el partido socialista como es la transferencia de la seguridad social

y antes políticas activas a mí me gustaría que en este caso señor lehendakari dejara de hacer un poco su gobierno el discurso lastimero este de victimismo de calimero sí

esta transferencia y yo porque me tengo que acordar que y estuvimos treinta años sin recibir

y la recibimos diez años después de la última comunidad autónoma que ya la había recibido y la recibimos después

como uno de los puntos que acordamos con el partido socialista de los primeros en aquel acuerdo de que de una vez tenían que venir las políticas activas de empleo y recuerdo que cuando el gobierno del señor lópez se puso a negociarlas ustedes que no estaban en el gobierno enredaron por atrás

porque como se iba a hacer esa negociación había que incluir más cosas

de algunos se empeñaron en que había que meter las bonificaciones de los contratos y les dijimos que eso nos iba a costar más de cincuenta millónes de euros al año pero como el señor zapatero era como era se lo aceptó y además como hizo los números dijo qué bien

y esa brillante actuación de su partido en aquella transferencia a día de hoy nos ha costado más de doscientos millónes de euros así sin más y en esta época de vacas gordas como estamos teniendo entonces

que se tardan en llegar pues habrá que preguntarse si es cosa de uno o cosa de dos o hay alguien que siempre se empeña en que no lleguen y yo en este caso de las políticas de empleo

y con las pasivas tengo que llegar a la misma conclusión que es que hay que dejar

hay que dejar sin cumplir alguna para poder decir que es que se incumple el estatuto

al informe que el gobierno nos mandó hace unos escasos meses a la ponencia de autogobierno un informe que se titula

que tiene ese título y que nos dice

en su disposición transitoria quinta el carácter unitario del régimen económico así como el respeto al principio de solidaridad

y no sigue diciendo ese

que como es de sobra conocido la lectura que se hace en relación a la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas está íntimamente condicionada por los criterios que la jurisprudencia constitucional hace de la normativa aplicable a la materia concreta susceptible de recurso es lo que dice ese informe

que ninguna de estas cuestiones cuando enumera lo que sería la seguridad social las funciones pueden ser en su regulación normativa susceptibles de traspaso y que incluso la propia gestión solo la gestión plantea problemas de delimitación esto lo dice su informe remitido

y en efecto y nos habla de sentencias del tribunal constitucional que cogen y lo definen y nos habla expresamente de la ciento veinticuatro barra ochenta y nueve

lo que no dice este informe de esa sentencia es que fueron a instancia la primera

que acudió al tribunal constitucional para que interpretara y delimitara y la segunda a instancias del gobierno vasco y que se estimó en parte

del año noventa y seis y del ochenta y nueve y de recursos planteados

y por lo tanto nosotros tenemos fijada por el tribunal constitucional y definidas cuáles son las materias objeto que pueden ser de ese traspaso de competencias de la seguridad social ahora

si el partido nacionalista vasco o el gobierno vasco desde el gobierno vasco o desde fuera del gobierno vasco lo que plantea son transferencias distintas a las ya fijadas y delimitadas por el tribunal constitucional

hablamos de otra cosa y evidentemente ningún gobierno constitucional de españa aceptar acordar algo que sea anticonstitucional y yo como usted siempre le oigo muchas veces aquí decir que ustedes respetan la ley

espero y deseo que a la hora también de negociar esta transferencia se respete la ley y no

nos inventemos cada uno luego ese informe de su gobierno tiene algo en lo que nosotros evidentemente no podemos estar de acuerdo cuando contempla

la solidaridad interterritorial porque aquí no estamos hablando ni de cupo ni de concierto económico

la solidaridad es intergeneracional es

y que paga las pensiones de los demás qué le quiero decir que no dice ese informe mire ese informe no dice como tampoco dice

los datos previsibles para españa son malos los de esta comunidad son peores

y si usted mira las previsiones del eustat

porque la generación de los sesenta va cumplir más de sesenta años dentro de cuatro años

dentro de cuatro años los de veinticinco años y sesenta años van a ser menos de los que somos hoy y van a ser mucho más de los sesenta pero esto usted lo sabe porque

qué no dice ese informe ese informe no dice que la comunidad vasca es deficitaria

diez años en el sistema de pensiones y qué es lo que no dice que éramos deficitarios con pleno empleo qué dice

desde hace cinco años empieza a ser deficitario eso ha ocurrido por la crisis económica y el paro pero es que nosotros somos deficitarios de antes solo este último año

sin contar los pensionistas que exportamos

sin contar las incapacidades temporales que según otro informe del profesor octavio se podían valorar en más de quinientos millónes de euros al año y claro esta es la tendencia que nosotros tenemos

y la crisis económica cada año incrementar el déficit propio en más trescientos millónes empezamos en ochenta millónes en dos mil seis

con datos del eustat hasta el dos mil doce porque luego han dejadode publicarlo

oiga vamos a ver cómo mejoramos este sistema hay que crear más empleo hay que incrementar la base de los cotizantes

eso no se lo hemos oído ni al partido nacionalista vasco en su asamblea de iruña

oído a este gobierno vasco qué les hemos oído a ustedes decir habrá que complementarlo con impuestos

y aquí yo sí le tengo que hacer una pregunta porque este debate en españa también está planteado

rescatar grabaciones de lo que hemos dicho como partido nacionalista vasco y en relación a todas las medidas necesarias a impulsar la reactivación de la economía y saber también en qué medida podemos trabajar en mejorar lo que puedan ser unas políticas pasivas de empleo se lo dijo

en el día de ayer en el debate mantenido en el día de ayer

y si hay que mejorar las transferencias de las que nos hagamos responsables las mejoraremos

las pensiones que actualmente cobran los vascos pues bien el gobierno vasco también y mucho y le voy a explicar por qué el fondo de reserva de las pensiones contaba en el dos mil once con sesenta y seis mil ochocientos quince millónes de euros a finales de dos mil quince

el gobierno español del partido popular ha reducido a menos de la mitad la denominada hucha de las pensiones a la vista de lo sucedido los últimos ejercicios se puede pronosticar que ese fondo puede quedar agotado en dos mil dieciocho es decir

más el estado acabará con la hucha de las pensiones es para estar preocupado por lo tanto le sugiero que no hagamos demagogia con este tema es un tema preocupante le preocupa a usted y me preocupa a mí

se le puede volver en contra sabe por qué porque la ciudadanía vasca tiene interiorizado que sus pensiones

la ciudadanía lo tiene interiorizado porque esto mismo es lo que ha sucedido con la salud la educación la protección social

universal de mayor calidad y con mejores resultados todo lo que hemos gestionado en nuestras propias instituciones desde la cercanía se ha gestionado mejor

incontestable segundo punto afirma usted en su interpelación que no está contemplado en el estatuto de gernika la creación del sistema propio de pensiones

lo puso con alusiones a la caja única y al principio de solidaridad yo no voy a discutir con usted lo que expresamente está recogido en el propio estatuto de gernika ley orgánica aprobada en referéndum e incumplida desde hace treinta y seis años sí me remito a la letra escrita y

que dice en materia de seguridad social corresponderá al país vasco a el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del estado salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma b la gestión del régimen económico de la seguridad social la disposición transitoria quinta del estatuto dice

los oportunos convenios mediante los cuales la comunidad autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la seguridad social dentro de su carácter unitario

esto lo dice la disposición adicional perdón transitoria quinta del estatuto según los procedimientos plazos y compromisos que para una ordenada gestión

y es lo que queremos negociar no solamente con el partido socialista obrero español sino hubiéramos querido negociar también con el partido popular de la lectura literal de los textos anteriores e interpretaciones se desprende por lo tanto primero

para la materialización de dicha gestión se establecerán los oportunos convenios en la comisión mixta de transferencias dentro de su carácter unitario y del respeto al principio

cómo cumplir con la previsión estatutaria y cómo hacerlo desde el diálogo y no desde la demagogia quiero recordar que los informes de transferencias pendientes están aprobados por este parlamento desde los años mil novecientos noventa y tres y mil novecientos noventa y cinco y en ambos casos

del régimen económico de la seguridad social no levantemos líneas rojas donde no las hay existen métodos y existen procedimientos señor damborenea para que euskadi gestione el régimen económico de la seguridad social como establece el estatuto de autonomía de gernika

el traspaso de esta materia pendiente tal y como ha demostrado para gestionar las demás transferencias es el sistema adecuado para cumplir el estatuto que significa cumplir la ley

en relación a la propuesta del partido nacionalista vasco bien en todo caso señor damborenea le digo que estamos hablando de un sistema uniforme de protección

suficiente e irregresivo convergiendo de un sistema de seguridad social integrado por un sistema público y un sistema complementario

a un sistema uniforme de protección social no desde posiciones

sino desde la practicidad de un acuerdo del traspaso del régimen económico de la seguridad social y esto es lo que dice el partido nacionalista vasco mire como lehendakari le vuelvo a remitir a la letra escrita la posición del gobierno vasco en esta materia ha sido enviada recientemente como usted ha hecho mención a esta cámara junto con el resto de informes

esta es una transferencia cuyo traspaso viene siendo insistentemente reivindicado por el gobierno vasco y que ha sido negado de forma sistemática por el gobierno español

reivindica la materialización de esta transferencia porque ello posibilitará el despliegue

completa e integral por parte de nuestra comunidad y termino volviendo al inicio creo que podemos coincidir en que el actual modelo de seguridad social en españa se encuentra severamente condicionado por una serie de factores que inciden en nuestra determinante o de manera determinante mejor dicho en lo que es la propia sostenibilidad futura y esos factores son factores que también nos afectan en euskadi factores que afectan en el conjunto del estado español el incremento de la tasa de dependencia determinada por el incremento de la esperanza de vida

las altas tasas de desempleo y la precariedad laboral la incertidumbre e inestabilidad económica son factores que provocan una sensible alteración del ratio

de vital importancia para el correcto y ajustado funcionamiento del sistema actual de reparto que sirve de base al modelo de seguridad social la traslación del actual sistema

sí no cabe duda de que sería necesario también en euskadi y digo también porque es necesario en el conjunto del estado español de todas maneras también en euskadi adoptar medidas como deberán adoptarse insisto en el estado

estamos dispuestos a plantearlo a analizarlo y a pactarlo ahora bien no estamos dispuestos a admitir que las dudas sobre el modelo de gestión futuro se utilicen como excusa para seguir demorando la transferencia a euskadi

si tienen responsabilidad ustedes también en el próximo gobierno español que no sabemos qué es lo que va a pasar ustedes me preguntaban hace quince días por podemos y yo decía que empeño con podemos parece que hoy la negociación

yo no sé qué es lo que va a suceder con el gobierno de españa y no sé cuál va a ser la responsabilidad que ustedes tienen pero en todo caso que se cumpla la ley y a continuación

la materialización de esta transferencia precisará la suscripción de un convenio de conformidad con la disposición transitoria quinta del estatuto en el que se determinarán los flujos financieros

y los aspectos presupuestarios deberá contemplar así mismo los aspectos económicos de las prestaciones la colaboración entre ambas administraciones y la atribución de las responsabilidades de cada una de ellas estamos hablando de convenio recogido en la disposición transitoria quinta del estatuto de autonomía de gernika

es que el desempeño por la comunidad autónoma de euskadi y de las funciones que el estatuto le atribuye sería beneficioso para la ciudadanía eskerrik asko

mire señor lehendakari lo de la mercancía el término de mercancía averiada que se la vengo oyendo desde hace un tiempo en esta materia a ustedes

no queremos lo que realmente nos corresponde

mercancía averiada o sea no queremos lo que viene en el estatuto y está delimitado por el tribunal constitucional tal como ustedes el gobierno vasco se lo pidió hace veinte años

es que no haya que volver a cambiar de gobierno para poner otro gobierno que sea capaz de negociar lo que viene previsto en el estatuto en la constitución y delimitado por el tribunal constitucional a petición

me habla usted del fondo de reserva me habla usted de que hay que aplicar el concierto económico pero vamos a ver yo es que cómo que hay que aplicar pero el gobierno vasco ha aportado algún euro a las pensiones o lo hemos aportado los ciudadanos con nuestras cotizaciones nosotros lo hemos aportado ya sé en que oiga y dice

sabe qué se le olvida a usted decir que en diez años los vascos no hemos aportado nada a ese fondo que desde hace cinco años disminuye sino que hemos recibido más de diez mil millónes del resto de los españoles

sin aportar ni un euro a ese fondo y ya sé que está en la cantidad que usted me ha dicho

y digo me salen porque también dicen y además nos corresponde parte de ese fondo con eso lo tenemos arreglado

del año dos mil cinco del año dos mil cinco y cuando estamos hablando de ese déficit

pero puedo sumar otros quinientos si quiere estamos hablando del veinticinco por ciento del presupuesto del gobierno vasco

actual y cuando usted me dice claro ahora hay fondos de prensiones privados claro

que usted parece que están planteando que les parece fantástico y ahora la duda es eso ya hay el que quiere lo tiene y el que no quiere no lo tiene

pues para eso es muy fácil se duplican las cotizaciones a la seguridad social de los que están cotizando pero la pregunta mía no iba por ahí la pregunta mía era ustedes parece que están dispuestos a que cuando no llega de un sitio se financie con impuestos y aquí yo le digo a usted que sí que juega el concierto económico porque nosotros recaudamos nuestros impuestos y si nosotros recaudamos nuestros impuestos y al final se llega a un acuerdo en el pacto de toledo se llega a un acuerdo en madrid

si es deficitario el sistema de pensiones como ustedes proponen hacer aquí eso se corrija tirando de los impuestos

tendremos que pagar con nuestros impuestos

y cuando yo le preguntaba a usted todas estas propuestas que ustedes hacen cómo se van a financiar porque esa era mi interpelación yo esto a usted no se lo he oído aquí

con la disposición transitoria del estatuto pues muy fácil aplicando lo que el tribunal constitucional dijo pero usted no quiere claro pero usted no quiere claro usted no quiere oiga pues si usted no quiere cumplir

tal y como le dijo a iniciativa del gobierno del partido nacionalista vasco en sumomento que es así claro ya no estamos en que es que allí no quieren claro es que es usted el que no quiere

hombre espero que no nos pase como las políticas activas que hay que cambiar el gobierno para poder recibirlas aunque luego ustedes por detrás en fin nos perjudique con su negociación sí sí más de doscientos millónes de euros nos lleva costando la broma

y el sistema de concierto en este caso no sirve

no sirve y lo sabe usted perfectamente como yo y cuando usted me dice y las previsiones los factores negativos que tiene la seguridad social en españa sí claro que tiene negativos de población

pero es que los nuestros son peores de población mire usted dice nosotros gestionamos muy bien allí gestionan muy mal ya se aplicará claro su presidente el señor

la transferencia del régimen económico de la seguridad social posibilitaría el diseño de un sistema integral de protección social que respondiendo a las necesidades actuales de las personas

y me llama la atención no la pregunta que usted me hace con qué fondos en función de lo que pueda ser la propuesta del partido nacionalista vasco que ya le he explicado

desde la practicidad pero me llama la atención el argumento que esgrime el gobierno español para incumplir el estatuto para incumplir el estatuto el gobierno español suele decir

porque es un traspaso deficitario y por lo tanto perjudicial para euskadi y si así fuera la transferencia del régimen económico de la seguridad social a euskadi sería beneficiosa para el estado entonces dónde está el problema cómo que no hemos aportado en diez años cómo que los vascos y vascas no hemos aportado hemos aportado igual que cualquier ciudadano o ciudadana del estado español

le pido que tratemos este tema con rigor con serenidad pero con seriedad que comience por asumir la necesidad de cumplir el estatuto de gernika

a los principios de unidad de caja solidaridad etcétera en sus intervenciones

apela al principio de unidad de caja que no está contemplado en la carta magna no está contemplado en la carta magna y es entre comillas un simple principio

cierro comillas según sentencia del tribunal constitucional ochenta y ocho barra dos mil catorce sentencia del tribunal constitucional al que usted alude

una iniciativa del partido popular en mayo de dos mil diez ante este parlamento pretendía defender la unidad de caja con motivo de la transferencia en materia de políticas activas de empleo

a euskadi y el servicio aun cuando estamos en un esfuerzo de mejora está funcionando se cumplió el estatuto y se mejorará el servicio a la ciudadanía y esto es exactamente lo que estamos proponiendo en relación a la gestión del régimen económico de la seguridad social le recuerdo que esta misma legislatura esta cámara ha aprobado dos proposiciones de no de ley y una moción en las que se reclama esta transferencia

lo ha aprobado este parlamento atienda a la legalidad que tanto

ni una supuesta ruptura del principio de solidaridad para negarse a cumplir el estatuto decir que la gestión de la seguridad social y las pensiones son insostenibles en euskadi significa asumir que en españa son insostenibles en mayor medida

tiene menos porque un sistema es más viable cuantas más personas coticen como se lo he dicho al señor maneiro y recuerdo en euskadi cotizan sesenta y cuatro de cada cien y en españa cincuenta y siete y le digo más euskadi ya que usted ha hecho referencia

en euskadi se hace un esfuerzo adicional en el ámbito de las pensiones

a su pensión de viudedad y este complemento se paga aquí y se soporta con los presupuestos vascos y demuestra con hechos nuestro propósito de garantizar

señor damborenea yo reitero que lo que procede es articular los mecanismos de diálogo y los convenios yo me refiero al convenio como fórmula recogido en la disposición transitoria quinta del estatuto de autonomía

en la comisión mixta de transferencias para hacer realidad tras treinta y seis años de incumplimiento una exigencia legal parlamentaria jurídica política

social mayoritaria si el gobierno vasco gestiona las pensiones van a estar más garantizadas y seguras gestionamos la sanidad la educación la protección social y están garantizadas y si gestionamos la seguridad social las pensiones

este parlamento ha sabido responder a la preocupación social

hay que reconocer que tanto esta cámara como el gobierno vasco la diputación

los partidos políticos junto con los sindicatos hemos entendido

la parada el aviso de parada indefinida de arcelormittal era algo más que el problema de una empresa

que hablamos del futuro de un sector arraigado en nuestra comunidad y del futuro en este caso de una comarca la de la margen izquierda

ya de por sí castigada con el desempleo así que el motivo de esta interpelación como señalamos en su contenido no es tanto pedir explicaciones sobre lo que

los viajes realizados las reuniones para interesarse por esta cuestión es más podemos coincidir en muchos casos podremos converger en la demanda de medidas antidumping frente a china o en la intervención en el precio de la energía para garantizar

no ya en euskadi sino en toda europa de lo que queremos pedir explicaciones es sobre el amparo y el acompañamiento a los trabajadores afectados

porque tenemos que decirlo es algo que hemos echado en falta en estas actuaciones

lo que negamos es que se hayan coordinado las actuaciones con esos representantes de los trabajadores en la declaración que unánimemente y sin discusión se aprobó por esta cámara a principios de mes había un elemento que era al menos tan importante como todos los demás decía el parlamento vasco destaca el esfuerzo realizado desde dos mil nueve por la empresa y el conjunto de los trabajadores lo que ha facilitado mediante el diálogo y el acuerdo diversas medidas de flexibilidad que han permitido superar todos los problemas que han ido surgiendo durante esos años pero también decía el parlamento vasco

y especialmente en zonas desfavorecidas se consiga con la implicación

por los que solicita al gobierno vasco que se coordine con dichos agentes en todas las actuaciones que lleve adelante para defender el mantenimiento de la actividad

o en cualquier otra de cualquier empresa de euskadi

a este pleno esta cuestión porque fue mi grupo quien propuso esta declaración y porque fuimos los socialistas quienes queríamos que el texto no fuera una mera muestra de solidaridad y de preocupaciones queríamos que se viera que contando con estos trabajadores que han aceptado diferentes medidas de flexibilidad para sacar adelante el proyecto a pesar de las dificultades que se han conocido desde el inicito de la crisis

desde el punto de vista social la situación de la parada mientras esta durara y a la vez trasladar a cuantas instancias sea necesario un plan de futuro de hecho esta aportación

con los que la secretaría general de mi partido idoia mendia se mantuvo en contacto desde el minuto uno

han sido reuniones con los sindicatos con el comité de empresa en la propia planta de sestao con la dirección

acompañados en todos los casos por esos representantes sindicales en vitoria en sestao

en donde alguien tenga las llaves para abrir puertas a las soluciones y son esos representantes los que nos han trasladado que de momento mientras dure la parada hay un mínimo de actividad posible

en la planta pero también que se pueden activar planes de formación para los trabajadores afectados por el ere planes que tienen que ver mucho con las competencias de este gobierno

se incluya a los eventuales en el expediente que no se olvide la situación de los mismos ya que de no tomar medidas urgentes se van a encontrar que en lugar de ser

en aplicación de los contratos de relevo sean trabajadores extinguidos en sus contratos también debe tenerse en cuenta cómo se van a ver afectados

todo esto tiene mucho que ver con el gobierno vasco con lo que puede hacer está bien organizar una mesa de crisis del sector está bien acudir a bruselas a exponer la preocupación por la competencia desleal que decía antes del acero chino

la actitud de dejadez absoluta del gobierno de españa en funciones ante una cuestión que deja en el aire el futuro de miles de trabajadores en euskadi y en toda españa hasta ahí podemos coincidir pero habría estado mejor que a la vez el gobierno se hubiera puesto a trabajar de forma coordinada con los representantes de los trabajadores

con las dificultades de interlocución que tienen con los agentes sociales les costó poner en marcha ni más ni menos que la mitad de la legislatura una mesa de diálogo social y en el año que lleva constituida una serie de acuerdos adoptados y mucha pereza del gobierno para llevarlos adelante

pero entendemos que es por una dificultad de su gobierno con esa interlocución pero es que también

atender los mandatos de esta cámara porque en noviembre del dos mil catorce en el monográfico sobre paro y pobreza acordamos lo siguiente el parlamento insta al gobierno a que implemente un protocolo especial para encauzar la situación de las empresas que atraviesan dificultades en este sentido entre otros aspectos

todos sus medios disponibles asesoramiento jurídico planificación estratégica líneas de ayuda a disposición de las y los trabajadores y o del

se comprometerá a analizar la situación y las posibles salidas y soluciones además dicho protocolo incluirá la garantía para que la representación

sobre la situación de la empresa y la posibilidad de elaborar planes de viabilidad y sus líneas de ayuda ha habido unas cuantas empresas en dificultades pero sigamos con el ejemplo de arcelormittal o ahora mismo desgraciadamente

en tubos reunidos dónde está el protocolo dónde está el asesoramiento jurídico y la planificación estratégica a disposición de los trabajadores cómo se garantiza

es que salvo que hoy se nos diga otra cosa que desconocemos algún acuerdo de gobierno que nos hayamos perdido alguna rueda de prensa

protocolo alguno no ha cumplido tampoco este mandato

los trabajadores tienen propuestas además de protestas los trabajadores plantean cuestiones que no dependen de china bruselas ni madrid dependen de lakua formación inclusión de los eventuales en los ere planteamientos para mantener un mínimo de actividad mientras esté en vigor

un mes después del anuncio de la parada algo sabríamos pero como no lo hay le preguntamos qué intenciones tiene su gobierno

parlamentario de articular un protocolo para asesorar a los trabajadores de las empresas

gaudela dicho todo esto y centrándome ya en la atención a los trabajadores en las empresas en situación en dificultades

todas las que se encuentran en dificultades las que se acercan al gobierno y las actuaciones desplegadas por este gobierno

a fin de facilitar información sobre todas las actuaciones públicas por un lado pero también prestando

mediadora en procesos negociadores planteados en el curso de la implantación de los mecanismos de ajuste que nadie deseamos pero que muchas veces

son por un lado la dirección de trabajo y seguridad social así como las delegaciones territoriales de trabajo del departamento de empleo y de políticas sociales la dirección del desarrollo industrial del departamento de desarrollo económico y competitividad además de los servicios de inspección de trabajo cuando son necesarios y los servicios

del consejo de relaciones laborales la actividad facilitadora en muchas ocasiones de despliegue de buenos oficios para la consecución de acuerdos entre las partes para la que se necesitan no pocas competencias y habilidades

una gran dedicación requiere sensibilidad

soluciones a situaciones realmente complicadas y en no pocas ocasiones lo conseguimos en no pocas ocasiones y creo que en esta afirmación todos con mayúscula todos los sindicatos y empresarios

no creo que nadie se siente desamparado con la acción del gobierno

entra en dificultades hacemos lo que podemos lo que no se puede es imposible la extrema complicación de las situaciones que se presentan habitualmente únicamente se solicita la intervención de las instituciones en momentos difíciles y delicados cuando las cosas van bien casi nadie se acerca a nosotros no está mal y en no pocas ocasiones de complicada solución

las afrontamos de forma singularizada particular y no es

por las propias particularidades de las crisis de las empresas y le voy a poner un ejemplo el procedimiento de mediación del preco

para los conflictos colectivos el único procedimiento que establece es uno veinte días de prácticas para todo tipo

actuaciones de reuniones conjuntas por separado con cada sindicato con cada uno de los grupos empresariales por teléfono por correo electrónico cualquier actuación es válida con tal de conseguir lo realmente importante tratar de alcanzar

lo que quería decir es que no me estaba refiriendo solo

desgraciadamente ayer veíamos las dificultades de tubos reunidos desgraciadamente todos somos conscientes que la

no depende ni siquiera de decisiones empresariales dicho así depende políticas que no se pueden adoptar ni siquiera aquí ni siquiera en madrid

vengamos a lakua primero a decir que sí hay cosas que hacer y que esa protocolización que en estos momentos niega señor toña debe existir para

una labor conjunta que pueda dar soluciones reales

a la que siempre hay que poner algo delante por eso le pedimos de verdad que se tomen en serio esta cuestión que tienen un mandato eta

egia esanda en el seno de la mesa de diálogo social por ejemplo sí hemos sido capaces de protocolizar estas actuaciones

no lo recibo de buen grado el que este gobierno no haya hecho lo posible para poner en marcha la mesa de diálogo social y trabajar con ella denodadamente pero bueno en la mesa de diálogo social se ha acordado con la representación del gobierno con confebask y con los sindicatos presentes con ccoo y con ugt la puesta en marcha de un protocolo para el reconocimiento

aplicable a las situaciones planteadas con ocasión de expedientes de regulación de empleo de extinción es decir de despidos colectivos se me puede decir ahora

con los trabajadores de acb en relación con esto y yo le digo están ellos en un expediente de despidos colectivos no afortunadamente

se trata de un mecanismo en todo caso que pone en marcha en el momento de la comunicación a la administración laboral a nosotros a la delegación territorial de trabajo para el conocimiento y evaluación de la formación acreditada por aquellos trabajadores que vayan a ser afectados

normalmente nuestras actuaciones tratan de situarse antes de que haya decisiones que ya son irreversibles de despido

se producen los despidos colectivos entonces participa el órgano

y también lanbide y los servicios correspondientes del departamento de educación básicamente a través del área de formación profesional como tiene que ser a tal fin entre otras cuestiones y para poder materializar de la forma más posible este acuerdo el gobierno aprobó

la organización procedimiento y evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación el decreto fue publicado unos días después dieciocho de noviembre y aprobado a propuesta conjunta de este consejero de empleo y de la consejera de educación política lingüística y cultura contempla un mecanismo de un proceso de reconocimiento de las competencias adaptado a los tiempos que requieren estos delicados procesos pretendiendo facilitar al máximo el nivel de empleabilidad de los trabajadores afectados por los despidos colectivos desde el mismo momento de su ingreso en la situación de desempleo

pero protocolizar las actuaciones en empresas en situaciones de crisis

el propio procedimiento y se lo he dicho antes de resolución de conflictos colectivos

lo que tratan es de restaurar una relaciones muchas veces rotas a un decir del derecho o a un decir del protocolo

la búsqueda de acuerdos los acuerdos están a veces

compartimos una preocupación sobre lo que está sucediendo en la evolución de la economía

en los últimos meses sobre todo desde el año dos mil doce se viene hablando a nivel general de la recuperación económica

siempre ese año llega y se aplaza al siguiente y en el dos mil catorce y sobre todo en el dos mil quince

hoy no hay ninguna noticia económica de ningún analista internacional de ninguna organización internacional que no hable de más dificultades sobre la economía hay dificultades económicas en estados unidos las hay en europa las hay en asia alemania tiene problemas financieros la ocde hoy mismo se pronuncia junto con el fondo monetarios internacional

compleja de interpretar porque por un lado dicen que hay que hacer más reformas y más recortes están exigiendo que haya una mayor inversión pública a su vez nos están planteando desde todos los observatorios económicos que el endeudamiento es excesivo y que por lo tanto hay que reducir el gasto en fin estamos yo creo que en una situación política económica sin demasiado norte

es motivo de anticipación política y de planificación política hace algunas semanas meses mario draghi decía aquello de que

pesa más el riesgo de actuar demasiado tarde

una experiencia en economía y en repercusión de la economía en lo social en los últimos años lo suficientemente dramática como para que no estemos viéndolas venir

evidentemente el país vasco tiene capacidad de actuación tiene presupuesto tiene competencias tiene posibilidades de acuerdos de entendimientos con instituciones con empresas en fin tenemos un marco un abanico de actuaciones importantes en ese aspecto desde una perspectiva de planificar y por supuesto no de agotar este debate aquí porque este tiene como he dicho una contestación mucho más compleja y mucho más profunda

en saber si hay alguna previsión si hay alguna planificación

le vamos a poder responder con actuaciones y con modificaciones que no estaban previstas por ejemplo

que junto a esa política presupuestaria hemos venido haciendo en los últimos tiempos los socialistas estamos preocupados y a la vez implicados usted sabe que nosotros

a la hora de hacer políticas para la ciudadanía y por lo tanto nuestra preocupación aumenta el valor y el tamaño precisamente por eso porque también estamos concernidos

eskerrik asko legebiltzarburu andrea permítame señora presidente y permítame señor prieto comenzar

manifestar como lehendakari y creo hacerlo en representación de todas y todos los presentes nuestra condolencia a la familia de hodei egiluz una vez de que se ha hecho oficial la confirmación del cadáver

al mismo tiempo que la condolencia creo también necesario ofrecer

por desgracia pueda hacer la familia y sus allegados

el acompañamiento y la solidaridad a todas aquellas otras familias que también cuentan con personas desfavorecidas espero que hayan ustedes aceptado también esta

intervención en representación de todas y todos ustedes señor prieto le agradezco cómo no

le agradezco su disposición a la ayuda y al trabajo de la mano entre todas y todos quienes tenemos una preocupación por lo que pueda ser la situación económica mundial internacional que nos pueda afectar en euskadi nosotros seguimos ciertamente como gobierno vasco

cuando menos como puede ser la incertidumbre en relación a la economía china los riesgos geopolíticos lo que pueda ser los efectos negativos del precio del crudo también de determinados sectores

estamos preocupados también por la incertidumbre política en europa y sus efectos también en lo que pueda ser la política económica el efecto de los tipos de interés negativos estamos preocupados por todas esas cuestiones que nos llevan a analizar puntualmente de manera permanente lo que es la evolución

diciendo que el gobierno vasco tiene estrategia y tiene una estrategia

consolidar un escenario de crecimiento y de empleo en el que estamos a pesar de las incertidumbres yo quiero hablar en un sentido optimista con cautela con mucha prudencia

partiendo de la constatación desde el inicio de que iba a ser un tiempo

y creo que eso es la estrategia que recoge los planes a los que el propio consejero de hacienda y finanzas ha hecho mención en la primera intervención

lo que ha sido la intervención del consejero de empleo y política sociales en respuesta a la pregunta anterior en cuanto a lo que son

como también de políticas de apoyo y acompañamiento a trabajadores de esas empresas en dificultades no improvisamos tenemos una política económica que creo que da frutos hemos superado la recesión y acumulamos ocho trimestres

porque sabemos que la base del crecimiento está en mantener estrategia está en mantener colaboración que usted ha brindado y yo lo recojo además

creo que euskadi está asentando la recuperación pese a que haya sectores en dificultades está asentando la recuperación décima a décima a empleo conocemos por lo tanto las incertidumbres pero mantenemos la previsión de crecimiento para los cuatro trimestres de este año y la estimación de crecimiento del producto interior bruto

y alcanzar un crecimiento medio anual del empleo equivalente a tiempo completo del uno coma siete por ciento

conociendo todas las dificultades desde luego vamos a mantener la estrategia pero también nuestro análisis puntual para reforzar esa estrategia con medidas puntuales eskerrik asko

o acciones de solidaridad que se puedan hacer con la familia

en relación a la pregunta lehendakari yo le voy a dar algunas referencias que me parece que hay que hablar sobre ellas más allá de que haya un plan

de desarrollo económico hoy la fiscalidad y la acción fiscal la recaudación se está comportando a la baja en relación con lo que habían sido previsiones

hoy hay sectores industriales también en la economía vasca que están directamente afectados por cómo es la evolución de la economía internacional y que a su vez salpican a otros sectores hacia el futuro bueno yo creo que tenemos elementos importantes de revisión

señor prieto efectivamente el gobierno sigue muy de cerca la realidad económica y empresarial de todos los sectores

solicitan que sean privados a mí me gusta actuar y hacerlo con un diagnóstico y con una estrategia compartida con la economía productiva lo hemos hecho en todos los sectores en el naval la energía automoción línea blanca bienes de equipo y también en la industria de la siderurgia y del acero

le reitero que la palabra clave es confianza nuestra previsión se mantiene y tenemos confianza en que la economía vasca siga creciendo y sigamos creando empleo de calidad

con todo tipo de agentes y también lo hacen los consejeros y consejeras entiendo que este trabajo también es una realidad

nos gustaría saber qué valoración hace usted de estos retrasos

se han hecho posteriores a diciembre nada más eskerrik asko lópez de ocariz andrea

que el sistema informático que ha habido que poner en marcha dada nuestra especificidad donde compartimos algunas de las actuaciones que tenemos que llevar a cabo entre diputaciones y gobierno nos ha llevado a una cierta dificultad y a un cierto retraso en la

pero hoy se encuentra en funcionamiento y alguno de los motivos por el cual ese pago se ha retrasado un poquito

año el ejercicio dos mil quince ha sido por una parte todas las modificaciones que se han producido

ya no es el mismo número de personas de trabajadores de baserritarras los que reciben las ayudas debido al cambio de normativa al cambio en la nueva pac hay expedientes que todavía no se han finalizado y algunos que tienen algunas dificultades y algunos errores por subsanar y por supuesto el principio de prudencia que nos ha guiado siempre no solamente ahora

siempre hemos realizado únicamente el pago del ochenta por ciento de la ayuda en diciembre del año correspondiente y se dejaba el veinte por ciento para posteriores subsanaciones si hiciera falta de tal forma que seguíamos las directrices de

cómo se encuentran en estos momentos pues es cierto alrededor del setenta y cinco por ciento han recibido esas ayudas en

puedan recibirlo el resto de todas maneras señalar le puedo dar los datos concretos a día de hoy ya se encuentran seis mil setecientos sesenta y cinco cobraron de ocho mil setecientos ochenta y seis en diciembre

ochocientos treinta expedientes que requieren alguna subsanación esperamos hacerlo a la mayor brevedad posible en cuanto se refiere a ese ochenta por ciento y el veinte por ciento restante de acuerdo con las directrices que tiene que además establecer el propio ministerio en el estado español

señora consejera ha puesto usted de manifiesto dos cuestiones por los que este retraso se ha dado

y adecuarlos quiero decirle señora consejera que si en algo gastamos dinero en el departamento de agricultura es en sistemas informáticos sobre cien millónes gastamos

si además de eso seguimos con problemas informáticos tenemos un problema muy serio de gestión señora consejera y luego me habla a que se ha dado la modificación de la pac sí pero esa modificación de la pac se ha dado aquí y en otras comunidades autónomas y por ejemplo una comunidad autónoma colindante con nosotros en el que los agricultores y ganaderos se están viendo continuamente

el quince de octubre hizo el pago del setenta por ciento del pago básico tal y como se reglamentó por la comisión el treinta de septiembre para la gestión un reglamento que está indicado para pagos para aquellos sectores que están en situación o porque hay sectores que están en situación especial de crisis y problema como era el sector lácteo en este caso y el sector de los cereales

adelantó el setenta por ciento del pago básico el cincuenta y uno coma siete por ciento del pago verde el veinticinco por ciento de profesionales jóvenes agricultores adelantó

a mil cuatrocientos cincuenta y tres ganaderos el quince de octubre usted cree señora

que juegan en la misma liga no señora consejera que no

y uno ha cobrado y el otro no y pasan los meses y uno no ha cobrado y el otro sí señora consejera que tenemos recursos

y no los utilizamos yo creo que siendo un año complicado para algunos sectores

y me temo mucho que esto no solo es cuestión de programa informático me temo mucho que es falta de liquidez de este gobierno falta de liquidez de este gobierno como ha pasado en otros sectores que están calladitos como el sector farmacéutico que quien ha pagado el mes de diciembre no el gobierno vasco verdad que han cobrado las farmacéuticas pero no

pues que siguen sin pagarse los cursos del dos mil quince y así señora consejera

es que eso llegue cuanto antes a los sectores y esto no es buena gestión es mala gestión y me parece verle muy relajada

explotaciones que tienen ligadas sus pagos a estas ayudas que tienen muchos vencimientos en el mes de diciembre porque saben que se les va a pagar esto y eso corre los meses y corren los intereses igual que pagarle las contribuciones a los ayuntamientos recargo

muchas otras circunstancias señora consejera creo que no han hecho ustedes el esfuerzo suficiente

y en mantenimiento y tantas cosas señora consejera creo que su gestión en este caso

con otra situación como si hubiéramos estado pagando en octubre en otras ocasiones en cualquier caso la situación de diputaciones forales y gobierno vasco las competencias repartidas no es igual

situación y queremos compartirlo con las diputaciones forales porque así lo hemos hecho siempre más datos por cierto porque a usted se le han olvidado pagos desacoplados por superficie

setenta por ciento de los pagos desacoplados por superficie se han hecho

cien por ciento de los que perciben la ayuda social al vacuno de leche se ha hecho evidentemente en ese ochenta por ciento porque siempre lo hemos

lópez de ocariz no me cuente que se encuentra en una situación tan terrible es verdad que tenemos que mejorar y que tenemos que hacerlo más eficiente

por el cual se suprimían del mismo la ley general de protección del medioambiente y la ley de empleo

y por lo tanto las únicas explicaciones que conocemos señor consejero son las que se han dado en la prensa sobre la retirada de la ley de empleo y alguna otra que se ha dado aquí a

la ley a la que nos referimos la ley de empleo cuando se presentó en el calendario legislativo decía que su objetivo era establecer los principios rectores de las políticas de empleo

en el discurso del señor lehendakari decía que entre las cinco prioridades ponía en segundo lugar los proyectos de ley orientados a la reactivación económica y decía ley de cajas de ahorro sin noticias ley de cooperativas en espera actividad comercial no se sabe estatuto de la mujer agricultora esa sí y la ley de empleo esa tampoco y el mismo lehendakari aseguraba en preguntas a euskal herria bildu el nueve de mayo de dos mil trece que plantearemos un calendario legislativo realista y que se pueda cumplir bueno ya estamos viendo que esto no es así

usted dijo que en primer término porque fue en dos tiempos que el borrador que había heredado de su predecesor no era lo suficientemente ambicioso y en un segundo tiempo

usted mismo no había sido capaz de llevar a buen puerto la iniciativa hoy a preguntas de la portavoz del partido popular en esta materia ha dicho que ha sido la modificación de la ley de empleo estatal

conturbado ese proceso y por lo tanto ha quedado también una vez más en el dique seco por eso volviendo al tenor literal de la pregunta se la formulo y le pregunto

cuáles son los motivos reales de la supresión del proyecto de ley vasca de empleo del calendario legislativo eskerrik asko

la verdad señor consejero es que tengo que decirle ya no es a cuestión del calendario legislativo que ya

rotundo fracaso yo quiero centrarme en las políticas de empleo

las políticas de empleo las políticas activas están siendo

un rotundo fracaso ustedes están poniendo más el acento en las políticas pasivas por qué no también es verdad pero claro cuando hacen apelación a las políticas pasivas y esta mañana lo he escuchado

a la transferencia de políticas activas transferencia de políticas activas que ustedes tienen además

de llevar en su programa electoral de las anteriores elecciones en la página cuarenta y tres

que ya no estaba averiada supuso en el ejercicio dos mil once y dos mil doce ciento treinta millónes de euros eso en cuanto a las políticas pasivas de las políticas activas estamos viendo realmente que por cierto

de manera fundamental que eso determina porque he contabilizado desde el dos mil tres al dos mil quince veinte modificaciones de la ley de empleo se modifica mucho esa ley si eso va a ser un problema para redactar la ley vasca pues creo que nunca la vamos a tener por eso yo le pido

qué es en qué medida porque en esas veinte modificaciones algo que se contiene es principio de anualidad

en los planes de empleo local y comarcal cabalgando entre diferentes ejercicios presupuestarios solo se han hecho tres convocatorias
y han dejado en una situación pésima entidades colaboradoras eskerrik asko itxaso jauna amaitu

respondo a su pregunta señor itxaso las políticas activas no son un fracaso son como todo mejorables

quisiera indicarle que la elaboración del señalado proyecto de ley tiene que tener presente sin duda el marco competencial que contempla el estatuto de autonomía y la constitución

pero es verdad que el desarrollo de la legislación laboral en materia de empleo dictada por el estado en los últimos años

cuyo texto el ultimo texto ha sido el de veintitrés de octubre y cambia continuamente

y lo circunscribe a aspectos organizativos que son muchos de ellos los que tenemos que desarrollar en la ley veintitres de octubre hace menos de cuatro meses

o nos guste menos lo que se pretende regular con la ley vasca de empleo además del diseño y configuración de un sistema vasco de empleo definiendo las instituciones que tienen que formar parte del mismo tanto públicas como privadas requiere en primer lugar

general básicamente de las instituciones públicas llamadas a formar parte del mismo básicamente las instituciones locales y forales para las que

celebrado el reciente proceso electoral lo que también ha determinado

a las políticas de empleo a las políticas activas de empleo debe contar como tampoco puede ser de otra manera con la aquiescencia de los agentes sociales sindicatos y organizaciones empresariales

al tiempo de salvaguardar ciertamente también la potestad decisoria del gobierno en todo caso la necesidad de adecuar a los cambios normativos superiores y de tener un texto en el que todas las partes se encuentren cómodas

de la tramitación pero quiero dejar muy claro que no hemos desistido en su elaboración reflexionada y consensuada en un sistema vasco de empleo y quiero dedicar el último minuto

a la señora garrido reconocer la limitación

no tenemos que verlo como una debilidad sino permítame decirlo como una fortaleza

no solo en el gobierno sino también en usted en su grupo y en toda la cámara

y trataremos todos espero que cuando se reconozca por cada uno de nosotros que no se ha podido hacer lo que se quería hacer con sinceridad veamos

sino una fortaleza un reconocimiento de nuestra propia humanidad limitada pero digna muy digna

en septiembre se celebró una reunión técnica entre representantes del departamento

con una serie de ayuntamientos el veinticuatro de noviembre de dos mil quince se celebró finalmente la reunión de la comisión interinstitucional para la inclusión social cuando se pudo hacer y en esa reunión el departamento presentó

el contenido de ese borrador incluía las propuestas varias propuestas para atender estos supuestos planteados en la proposición
no de ley veintitrés barra dos mil quince eskerrik asko toña jauna

del consejo institucional para conocer qué cambios proponían en el decreto de la aes

no entendemos porque en más de una ocasión hemos oído a una portavoz del grupo parlamentario que lo sustenta en este pleno decir que se estaba modificando ese decreto con lo cual confiábamos en ello y esperábamos

podamos llegar a más personas de las que ahora llegamos pero puede haber tres motivos por lo que esto se ha incumplido entendemos uno

no hablen cuando se firmen las transaccionales no creo que sea eso no conocían la dificultad que entrañaba esta modificación del decreto ese puede ser otro motivo o firmaron este acuerdo

una de las tres cosas si realmente existen dificultades para modificar ese decreto ustedes también podían haber solicitado comparecencia en la comisión y explicarnos

como llegamos aquel día pero es lo que ustedes no han hecho ni modifican el decreto la orden va a ser la misma y tampoco nos lo han contado por lo tanto incumplimiento por todos los lados

dado que el mandato del parlamento se refiere únicamente al decreto de las aes estamos en la posibilidad de atenderlo pero respetando la jerarquía normativa y sin cuestionar el conjunto del sistema de garantía de ingresos no es fácil se ha dado inicio a la tramitación del decreto de modificación de aes con una nueva versión del primer borrador

de vivienda y la ley nueve barra dos mil quince de veintitrés de diciembre por la que se aprobaron los presupuestos generales de la comunidad autónoma que prevén una nueva prestación económica de vivienda ahí estarán

constreñidos nuestros presupuestos la nueva versión del decreto de modificación de las aes está siendo examinada por los derechos jurídicos de la

una vez que la nueva versión del decreto tenga la conformidad de esos servicios jurídicos el texto tendrá que ser sometido a los informes a los que se somete cualquier decreto a las audiencias correspondientes a los ayuntamientos a las entidades que gestionan las aes

etcétera tras el examen de los informes y las alegaciones el texto resultante tendrá que

previamente a su aprobación por el consejo de gobierno no le digo nada nuevo soy consciente todos somos conscientes de que las cosas tendrían que ir más rápido de lo que van muchas veces

y en este caso no ha sido voluntad el no aplicarlo y el retraso se debe simplemente a que cuando se hace un mandato después

las aplicaciones de los mismos en cuanto esté todo esto el decreto y el mandato parlamentario

cuando nos hemos encontrado con el resultado del análisis que la

ha puesto encima de la mesa uno de cuyos testimonios

me insultaban me decían que era un inútil un pringado y que ojala me muriera me hicieron sentir una mierda no podía dormir tenía estrés

me sentía solo no tenía apoyo de nadie un día lo conté a mis profesores y no le dieron importancia entonces me empezaron a pegar

los libros la mochila llegaba con moratones a casa pero nunca conté nada a mis padres

como dice la ong save the children el acoso

es violencia y no podemos justificarlo de ninguna manera

genera un sufrimiento que deja fuertes secuelas y en ocasiones puede conducir

no la culpamos de esto señora uriarte el maltrato entre iguales

es una realidad que sin duda es sufrido en los colegios y escuelas desde siempre y que durante mucho tiempo

lamentablemente como algo normal dentro de aquella cultura del silencio que llegó a imponerse y que ha sido una de las razones por las cuales este maltrato se ha perpetuado hoy esta situación

y sabemos que la clave fundamental respecto a este problema

no hay ninguna conducta relacionada con el maltrato que pueda aceptarse o disculparse porque sabemos que incluso

con el maltrato de tipo verbal y que en muchas ocasiones se consideran menores son frecuentemente

que llegan hasta las agresiones físicas durante mucho tiempo la actuación

se ha vinculado exclusivamente a la víctima y al victimario y sin embargo hoy se entiende que además son participes de este tipo de situaciones

testigos directos que presencian el hecho e incluso los indirectos que van desde el personal docente las autoridades educativas

la solución de este problema por lo tanto no puede no debe estar enfocada a una o dos personas en particular sino que debe involucrar a toda la comunidad

hacia las situaciones de acoso y maltrato entre iguales en los centros escolares de forma

hemos desarrollado más investigaciones y estudios sino que también hemos puesto en marcha programas educativos específicos dedicados a la prevención de este tipo de conductas

el departamento de educación ha venido mostrando desde hace mucho tiempo su preocupación e interés por atajar este problema hasta el punto de que lo convirtió en uno de los ejes estratégicos de análisis e intervención en los centros así además de las medidas y propuestas especificas de carácter educativo

en disponer de datos periódicos sobre la situación y evolución de este fenómeno por eso

ya se llevó acabo la primera investigación sobre maltrato entre iguales en la enseñanza secundaria obligatoria

a partir de un cuestionario sobre violencia escolar elaborado para el estudio

queríamos disponer de datos comparativos con otros contextos este estudio se aplicó en el dos mil cinco en el último ciclo de primaria

incluso la comisión de educación del parlamento vasco fue consciente de este problema y con fecha dos de marzo de dos mil siete

y fruto de esta solicitud se realizaron nuevos estudios en dos mil ocho y en dos mil nueve

con objeto de poder medir la evolución del maltrato escolar entre iguales en euskadi

hasta el momento se llevó acabo en el curso dos mil once y dos mil doce y fue presentado en la comisión

en este estudio se constataba un cierto incremento de las situaciones de acoso escolar en nuestros centros escolares en los últimos meses estamos asistiendo a una reiteración de noticias relacionadas con situaciones de acoso escolar en nuestros centros hay una sensación de que este problema va en aumento

el departamento de educación política lingüística y cultura no nos ha vuelto a dar información precisa sobre la situación del maltrato

por ello señora consejera nos gustaría conocer cuáles son sus intenciones a este propósito cómo lo ve cuál es su propia versión de los hechos
y si tiene intención de realizar un estudio en las próximas fechas nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea erantzuteko

para facilitarles la tarea a los centros la administración educativa ha procurado siempre poner a su disposición los necesarios recursos materiales y ayuda

dicha guía termina los pasos que se deben seguir en los casos en los que se detecte o se tenga conocimiento

una guía que sin duda sirve de gran ayuda al profesorado y equipos directivos

esta compleja problemática como usted sabe la guía ha sido periódicamente actualizada en dos mil siete y dos mil once para adaptarse a los nuevos tiempos y necesidades

para lo que ha tenido en cuenta las sugerencias y aportaciones de los centros de los diversos servicios de la administración educativa y de otras instituciones así como la información derivada de la investigación y los estudios realizados

se haya la sustitución del término maltrato entre iguales por el de acoso escolar el cambio del término obedece a la necesidad de evitar confusiones detectadas en los centros

que si bien requieren el adecuado tratamiento no se ajustan a las características de este tipo de conductas esta guía junto con la labor de los centros educativos y el seguimiento e intervención de la inspección de educación en este campo

entre iguales que debe imperar en todos los centros alde horretatik

el acoso escolar forma parte del plan de gestión de la inspección que incluye todas y cada una de las actuaciones que se llevan a cabo

que nos ayuda a conocer los posibles casos con celeridad y tomar las necesarias medidas de inmediato

si bien no ha realizado un estudio específico sobre la situación de acoso entre iguales en los centros de educación primaria y eso ha seguido manteniendo el interés por esta investigación de hecho

que se ha reflejado en su plan de trabajo y tiene previsto abordar próximamente la redacción del informe sobre el acoso con datos comparativos de los años dos mil trece y dos mil quince

por último también cabe destacar el convenio firmado con el departamento de seguridad en dos mil trece como sabe mediante dicho convenio se pretende profundizar en las acciones preventivas ante situaciones diversas como el bullying ciberbullying drogas peligros en internet

lo cierto es que según hemos podido comprobar en las reuniones de seguimiento del convenio estas actividades han tenido muy buena acogida voy a trasladar algunos datos significativos

el departamento de seguridad ha realizado ochocientos cincuenta y ocho actividades divulgativas en centros educativos solo el curso pasado

sobre todo alumnado pero también las familias y profesorado en dicho curso

colaboraron con ciento sesenta y cuatro centros educativos entre la demanda de los centros educativos a la hora de solicitar la colaboración de los expertos de seguridad destaca con diferencia las charlas relacionadas a los peligros en internet

el alumnado participante valoró con más de cuatro puntos sobre cinco las charlas divulgativas de los diferentes contenidos que ofrecía el departamento de seguridad

como puede ver son muchas las actuaciones que se están llevando a cabo en el ámbito de sensibilización y formación de prevención de asesoramiento a los centros de elaboración de guías y modelos y también

por supuesto somos plenamente conscientes de que existe acoso escolar en los centros

sería irresponsable por nuestra parte conocemos el informe publicado por save the children esta semana este informe refleja claramente que la situación de euskadi

mencionaré algunos datos el porcentaje medio de niños y niñas víctimas de acoso en el estado es del ocho coma uno por ciento mientras que en euskadi es el cinco coma tres por ciento en lo referente al ciberacoso el porcentaje medio a nivel estatal es del cinco coma ocho por ciento mientras que en euskadi es del tres coma seis

sobre la realidad ya empieza a ser curativa

cuando ha tenido posibilidad en estos años de hacer una evaluación de diagnóstico ha sido medir con algunas preguntas aisladas tanto en cuarto de primaria

no podíamos hacer una actuación comparativa con lo que habían sido los anteriores análisis

y toda la secundaria al ser precisamente estas etapas aquellas en las que concurren más casos de maltrato escolar hemos de dar por bueno el estudio de save the chindren a las cifras hemos de dar por bueno el informe de la fiscalía en cuanto

que nos dice que el número de denuncias por acoso escolar ha experimentado un importante aumento

se han registrado seis expedientes en los que aparecen jóvenes que manifiestan ideas suicidas o ejecutan actos autolíticos de destrucción

además señala hubo un suicidio consumado aunque no aparece registrado al no haber habido denuncia hemos de dar por bueno

y esto pues usted me ha dicho que también pero yo lo que le quiero decir es que en el año dos mil doce efectivamente

se mide hasta el extremo es decir cuando generamos el observatorio de la convivencia del que no le he oído nunca hablar el observatorio de la convivencia

es precisamente este estudio del año dos mil doce que marca el índice de maltrato tanto en primaria como en secundaria

mide en ese maltrato que se ve que va corrigiéndose de primaria a secundaria mide el maltrato verbal el maltrato físico agresión a las pertenencias exclusión social y ciberbullying

además de esto que le he comentado se mide también el acoso sexual esto proporciona datos

para efectivamente hacer una comparativa es verdad que usted dice dice

mal situada la comunidad autónoma vasca en esta materia y nos alegramos pero claro

fíjese usted porque esta es una cuestión que se sufre personalmente y tenemos que tener

el estado de alerta en los centros escolares como para que no ocurra

para que no ocurra de ninguna de las maneras cuando sobre todo en este momento por las redes se transmite ese sufrimiento de mayor manera por eso le digo señora uriarte que sería muy interesante que usted diera la directriz a su instituto de evaluación

una medición que fuera comparativa con respecto a los años anteriores tenemos una del dos mil doce haga una comparativa

anteriores y dos mil dieciséis porque eso no solamente importa a la hora de que usted tenga sus propios datos no solo importa a esa hora

aumenta la tensión positiva en los centros y mejora la situación

vistos los informes de los años dos mil ocho y dos mil nueve en los que prácticamente se repitieron los datos

por un lado porque según sus datos y según el proceso seguido en otras investigaciones relacionadas con este tipo de fenómenos era más adecuado y pertinente dejar pasar cierto tiempo entre un estudio y otro de forma que se pudiera medir más claramente su evolución y por otro porque de esta manera se reducían las molestias continuas que este tipo de investigaciones generan en los centros escolares en todo caso como le he citado previamente el isei ivei y también este departamento han seguido manteniendo el interés en esta investigación

además de la labor de investigación que se continúa realizando desde el isei ivei

labor que nos permite detectar cualquier variación tanto en el número de casos

por género o edad o incluso en la tipología de los casos quisiera aprovechar esta ocasión para presentar los datos más significativos en el pasado curso dos mil catorce dos mil quince se denunció un total de doscientos sesenta y ocho casos

es decir en un veinticinco por ciento de los casos denunciados conviene señalar que si analizamos la evolución de los cinco últimos cursos el número de casos denunciados ha ido aumentando de manera considerable

a doscientos sesenta y ocho en el último curso sin embargo el porcentaje de casos efectivamente confirmados no ha ido disminuyendo

al veinticinco por ciento en el curso pasado es decir solo uno de cada cuatro realmente es acoso consideramos que esta evolución es realmente positiva

los casos reales de acoso escolar van disminuyendo esta tendencia continua también en el primer trimestre del presente curso si bien cabe destacar que se ha producido una evolución

en el primer trimestre la inspección de educación ha recibido ciento cincuenta y cinco denuncias o informaciones de acoso frente a los ochenta y dos en el mismo periodo del año pasado

sin duda un dato llamativo que responde a un aumento significativo de la concienciación y sensibilización con respecto al acoso escolar

según señalan desde inspección suele ser habitual que el protagonismo mediático de un caso de acoso tenga reflejo en el incremento de las denuncias recibidas

y resulta necesario esperar a contar con todos los datos del curso puesto que lo habitual suele ser que las cifras se estabilicen garrantzitsuena zera da

con respecto a la tasa de temporalidad los propios sindicatos conocen perfectamente que la interinidad responde

en cuanto a la cobertura de bajas y sustituciones tenemos en la actualidad un marco de condiciones considerablemente más favorables para la atención del alumnado la organización de los centros y el desarrollo de la labor de los docentes además se siguen manteniendo las condiciones recogidas en el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del decreto de dos mil diez

aportará mayor estabilidad al sistema educativo vasco y ofrecerá la posibilidad de un empleo estable y de alta calidad a casi seiscientos personas en todo caso he de insistir

por ello este gobierno continuará con las convocatorias de ofertas de empleo público con el fin de conseguir una mayor estabilidad del sistema y una mayor calidad de la educación y de la formación de nuestro alumnado

se lo agradezco lo conozco bien soy uno de ellos igual usted ha tenido que leer los datos por otro lado nos ha dado sus apreciaciones sobre los datos de la ope que realizamos en el año dos mil quince y me ha llamado la atención aunque usted no lo ha nombrado aquí que en la justificación de la pregunta ha calificado usted de una ope irrisoria

que han participado gustosamente y merecen todo el respeto una ope convocada y celebrada como será la próxima

mire el gobierno no hace demagogia en temas de empleo no jugamos con el esfuerzo ni con la ilusión de las personas que persiguen un puesto de trabajo estable usted y los miembros de esta cámara saben que si no hubiéramos respetado las tasas de reposición impuestas por el gobierno de españa y contra las que en todo momento nos hemos mostrado contrarios

como ha ocurrido en más de una comunidad y hubiera sido hoy mil puestos menos de empleo estable en osakidetza de esa lista que usted ha leído aquí

usted ha pedido en varias ocasiones más plazas a nosotros también nos gustaría convocarlas

ha sido desgraciadamente respetar la tasa de reposición

o ninguna aunque no le guste escucharlo

en múltiples reuniones con la representación social en múltiples reuniones y además ha respetado los principios de igualdad mérito y capacidad no es de despreciar mil puestos de trabajo estables en la actual coyuntura económica le agradeceré que me diga usted

pública o privada en cuanto a la nueva ope de osakidetza a la que usted se refiere mire es un compromiso firme del gobierno

en el sistema sanitario de euskadi y lógicamente lo vamos a llevar a cabo

y en perfecta sincronización con el desarrollo de la ope actualmente en marcha

ditut las personas que se han presentado se han presentado voluntariamente señora ubera la nueva oferta

para no perder la tasa anual de reposición de efectivos porque a nosotros nos preocupa el empleo estable atendiendo a dicha tasa de reposición

las de promoción interna la distribución de las plazas por categorías profesionales y las bases de convocatoria

como se hizo en la anterior las plazas se centrarán en aquellas categorías que no han sido convocadas

por un tema de equidad esta propuesta se ha presentado ya el pasado diecisiete de febrero en la mesa sectorial a los sindicatos el desarrollo y la realización de las pruebas ya lo hemos dicho no se realizará este año con lo que evitaremos el cruce de procesos

actualmente en curso en definitiva el gobierno apuesta por el empleo estable y de calidad

continuará celebrando ope con las máximas garantías jurídicas para consolidar empleo y garantizar el futuro de sus servicios

a mí me gustaría sacar todas las plazas disponibles pero vamos a sacar las que seamos capaces de cubrir con garantía de seguridad jurídica por respeto a las personas
que aspiran a trabajar en osakidetza eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

gracias señora presidenta señora consejera la resolución diecinueve de enero de dos mil dieciséis publica el convenio de colaboración entre el ministerio de agricultura alimentación y medio ambiente en las confederaciones

y la agencia vasca del agua por el que se encomiendo diversas actividades en materia de dominio público hidráulico

y es por lo que le pedimos a la señora consejera una valoración de este convenio eskerrik asko lópez de ocariz andrea oregi andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok efectivamente como bien conoce su señoría puesto que así está expresado en el exponendo del documento del convenio de colaboración que ha citado el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cuatro el entonces ministro de obras públicas transportes y medio ambiente y el departamento de transportes y obras públicas

virtud se encomendó a la comunidad autónoma del país vasco la tramitación de autorizaciones relativas al dominio público hidráulico así como la policía del mismo

hidrológica dicho convenio todavía permanecía parcialmente vigente en dos mil quince en virtud del principio de colaboración entre las administraciones el ministerio de agricultura alimentación y medio ambiente y el gobierno vasco a través de nuestro departamento consideraron de interés definir un nuevo marco general que sustituyera al establecido en mayo de mil novecientos noventa y cuatro una vez pasados prácticamente veintidós años

la actuación de las entidades interesadas en el ámbito territorial de las cuencas hidrográficas que vierten sus aguas al mar cantábrico y a la cuenca del ebro había habido muchos cambios legislativos a partir del año mil novecientos noventa y cuatro hasta aquí tanto a nivel estatal como autonómico

y también a reforzar las medidas de ordenación de la actividad administrativa tendentes a incrementar la eficacia en la gestión de las funciones encomendadas hemos tenido muchas y largar reuniones entre el ministerio entre la dirección general del agua las confederaciones hidrográficas las agencia vasca de agua ura

por lo que entiendo que a partir de ahora la administración hidráulica será más eficaz y más eficiente por tanto me pregunta usted por mi opinión

efectivamente señora consejera como usted ha dicho es un convenio que yo interpreto como generoso con el gobierno de españa el gobierno

el ministerio la dirección de aguas abonará todos los años durante cuatro años

a ura la confederación hidrográfica del cantábrico doscientos mil euros al año a ura y la confederación hidrográfica del ebro abonará otros doscientos mil euros al año a ura total setecientos cincuenta mil al año

a ura por la tramitación de unos expedientes no se fija el número de expedientes no sabemos si son

en cualquier caso por eso interpretamos que es un convenio generoso y un convenio generoso que además singularmente está al margen del cupo con lo cual entendemos que

mal entendemos que ha habido ese acuerdo lo que a mí me gustaría

que este convenio está en estas circunstancias que se firmó el veintitrés de diciembre gobierno en funciones que se ha publicado el diecinueve de enero gobierno en funciones

portavoz del gobierno cuando sale a explicar a los ciudadanos

francamente alarmado porque tiene grandes dificultades para llegar a acuerdos con un gobierno en funciones

se ha firmado con un gobierno en funciones y se ha publicado con un gobierno en funciones por lo tanto el gobierno en funciones del señor mariano rajoy funciona trabaja y esta es una prueba de ellas hay otras

de ellas y además lo que queremos es que sea una administración leal y que no diga mentiras por lo tanto el gobierno del señor rajoy ni en plena actividad ni en funciones que también está en plena actividad

porque ha sido muy generoso durante toda la legislatura y lo está siendo igual de generoso en funciones por lo tanto queremos un gobierno que sea leal

los ciudadanos a los que dice que sale a informar que yo interpreto que desinforma intencionadamente y que sea leal con las administraciones

mire señora lópez de ocariz no sé si es un convenio generoso o no es generoso yo creo que hemos estado negociando durante mucho tiempo este convenio y hemos alcanzado este acuerdo ya le dicho que yo estoy

porque nos va a permitir trabajar mejor de aquí en adelante pero también le he dicho en mi primera intervención que estamos hablando de la renovación de un convenio porque ya existía un convenio de encomienda del año noventa y cuatro veintidós años prácticamente desde que se firmó aquel convenio durante esos veintidós años hemos reiterado a los diferentes responsables de los ministerios que ha habido en estos veintidós años y nunca hemos conseguido que nombrasen ni siquiera a los miembros

de la comisión de seguimiento que establecía esos sucesivos convenios por tanto estoy contenta de que se haya firmado este convenio

en que se cumpla porque eso nos permitirá trabajar mucho mejor y además aporta esa parte

porque cabe destacar también que desde el año dos mil cuatro parte del convenio no se venía cumpliendo en cuanto a la compensación económica de la aplicación de los cánones del agua

porque el ministerio unilateralmente decidió dejar de abonarlos hemos negociado yo personalmente con muchos ministros y

y por fin hemos firmado el veintitrés de diciembre pero

aquel gobierno y el nuestro tres largos años y por fin

este parlamento aprobó en comisión parlamentaria una enmienda transaccional que decía el parlamento vasco insta al gobierno a que en un plazo no superior a seis meses

para la protección y conservación de los valores ambientales y patrimonio natural de la zona de uribe kosta butrón a fin de que pueda ser

en coordinación con la propuesta de la red marina propiciada por la administración del estado

aprobada con ningún voto en contra los votos favorables de eh bildu partido popular y partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco que es el partido que sustenta el gobierno

señora rojo de conformidad con el artículo veintinueve punto dos de la ley cuarenta y dos barra dos mil siete de trece de diciembre de patrimonio natural y de la biodiversidad

si se solapan en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos las normas reguladoras de los mismos deberán ser coordinadas para unificarse en un único documento integrado también

la prioridad absoluta que hemos llevado desde el departamento que dirijo ha sido la implementación completa de la red natura dos mil en euskadi designando la totalidad de las cincuenta y dos zonas de especial conservación las zec y estableciendo las medidas de conservación de esas cincuenta y dos zec y de las

terrestres de nuestro territorio esto está suponiendo un esfuerzo y dedicación muy intensos por parte tanto de los servicios técnicos de nuestro departamento como de los servicios técnicos de las diputaciones forales y en el caso que nos ocupa la de bizkaia

a dejar para una segunda fase de planificación todo aquello que no está en esta primera fase de conversión de los espacios que ya estaban declarados

que usted conoce bien este proceso de designación de las cincuenta y dos zec de las cincuenta y

año dos mil dieciséis y a partir de ahí seguiremos con otras propuestas de incorporación o también ampliación de espacios y en el caso de uribe kosta butroe tal y como

esperamos incluirla para dos mil diecisiete eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea rojo andrea zurea da hitza

sí gracias presidenta bueno entre zec lic y zepa no ha contestado a la pregunta

y usted me ha puesto hoy la misma excusa que me lleva poniendo en cada una de las diferentes preguntas parlamentarias que este grupo parlamentario le ha hecho pero que también le ha hecho eh bildu

y yo le digo que la excusa de solapamiento es una excusa porque jurídicamente es posible

así por ejemplo una marisma puede estar protegida por el convenio de ramsar y al mismo tiempo puede ser declarada biotopo protegido conforme a la legislación vasca por ejemplo

y sus marismas están protegidas además por el convenio ramsar

que en este parlamento no hacemos más que debatir y tomar acuerdos por parte de los diferentes grupos para que el gobierno

forma parte de estos acuerdos que son los acuerdos de los que forma parte para evitarse los problemas en la comisión parlamentaria

de esto mismo hablamos ayer pasa con las dot pasa con esto porque usted desde el minuto esta iniciativa en el parlamento a cada una de las preguntas parlamentarias su respuesta ha sido lo protegeré pero como quiera o como considere este parlamento ha decidido que queremos

sabemos que hay otras formas otros instrumentos de protección pero este parlamento en el derecho que nos otorga y sobre todo

por ocurrencia entendemos que la mejor protección es la figura del biotopo su partido opinaba lo mismo y le puedo decir cronológicamente todo lo que ha venido pasando con el tema del biotopo

en septiembre del dos mil nueve ya hay una asociación naturalista que empezó a trabajar con el tema

se empieza una campaña de ecologistas a favor de la creación del biotopo en dos mil diez hay una reunión de la viceconsejera para empezar a declarar el biotopo protegido

por unanimidad decidió que quería el biotopo protegido para la zona de uribe kosta gobernando siempre el mismo partido

por tanto la pregunta es por qué este gobierno no cumple los mandatos parlamentarios

para hacer política pues igual lo que tienen que hacer es disolver el parlamento porque no hacemos más que debatir y acordar para que ustedes hagan lo que les de la gana los montes de triano les interesó y lo protegieron

además del régimen cautelar que está establecido en la orden de inicio de septiembre del dos mil doce por el que se inicia la redacción del porn también tenemos la zec de la duna de astondo que fue declarada

la legislación de costas la normativa sobre evaluación ambiental y además le son de aplicación

el plan territorial sectorial de protección y ordenación del litoral el plan territorial sectorial de zonas húmedas el plan territorial sectorial de márgenes de ríos y arroyos

dos mil veintiuno los planes de gestión en bizkaia del visón europeo y del cormorán moñudo por tanto yo creo que el espacio

está perfectamente protegido y además le he dicho en mi primera intervención que estamos trabajando en la designación de la primera

en zec que usted conoce bien en esos cincuenta y dos

dentro de la directiva hábitat y que obligatoriamente deben ser declarados

una vez terminado todo ese trabajo que estamos elaborando

ellos los que luego gestionan todos los espacios naturales y por tanto todos los trabajos deben de ser en colaboración como también reiteradamente se nos recuerda en esta cámara y así lo hacemos estamos avanzando con ellos de común acuerdo para en la siguiente fase continuar con nuevos espacios como puede ser toda esta zona partiendo de la zec de la duna de astondo que será ampliada incorporando todo esos espacios que están

no son más que un pequeño porcentaje de las hectáreas que se dan finalmente una gran zec en esa zona